lehendakari jauna egun on denoi comparezco para presentar el proyecto de ley en materia de adicciones

el nueve de diciembre de dos mil catorce y que se presenta hoy en el pleno para su aprobación como ley de atención

creemos que es precisamente esta el área de actuación prioritaria

y drogodependencias de hecho nuestra propuesta es intervenir desde un enfoque de salud pública en aras a optimizar la efectividad de la prevención y la promoción

me gustaría recordar que hace tres años este pleno aprobó el plan de salud dos mil trece dos mil veinte

intersectorial a las políticas públicas a desarrollar y para mejorar

me refiero al enfoque de salud en todas las políticas como estrategia prioritaria junto a la promoción de conductas saludables para dar respuesta a las necesidades

ayudará a abordar el fenómeno del consumo de alcohol por parte de los y las menores que como ustedes saben es una de las cuestiones que nos ha preocupado y ocupado a lo largo de la legislatura también abordar las denominadas adicciones comportamentales

no recogía así como nuevos productos como los dispositivos

y sobre todo a profundizar en los derechos y deberes de las personas consumidoras de drogas

conductas excesivas con riesgo de generar adicciones como sus señorías conocen el abordaje de las adicciones ha sufrido enormes cambios

usos y consumos así como la percepción social del fenómeno todos recordaremos cómo en aquellos años sesenta setenta empezamos a ver consumos nuevos y muestras de consumo protesta se dieron también los primeros síntomas de alarma

consideraba conductas normalizadas el consumo de alcohol y de tabaco de ahí pasamos a los ochenta década en la que se inició la alarma social junto a una gran inseguridad ciudadana asidua a las drogas

lo que trajo consigo respuestas de orden público pero también entonces

el fenómeno afectó sobre todo a personas jóvenes y vino acompañado de la epidemia

la respuesta institucional en euskadi fue intensa en el ochenta y uno se creó el dak centro coordinador de drogodependencias en el ochenta y dos

en el ochenta y cuatro la puesta en marcha de las comisiones interdepartamental y parlamentaria en el ochenta y seis

y en el ochenta y siete el libro blanco de drogodependencias de euskadi urtebete geroago aho batez onartu zen legebiltzar honetan

trajeron consigo nuevas drogas de síntesis el descenso de consumo de heroína y cocaína el ascenso del consumo de alcohol entre los jóvenes

ante el fenómeno así como también una normalización de la respuesta a las distintas necesidades que surgen de las adicciones esto quedó patente en la ley vasca

y que apostaba por un abordaje global por una estrategia comunitaria y por la planificación y coordinación entre las diferentes administraciones públicas euskadiko

botere publikoei a partir del año dos mil se consolida la lucha contra el tabaco surgen nuevos patrones de consumo de alcohol como el botellón y el consumo intensivo

al tiempo que irrumpen dispositivos como el cigarrillo electrónico en estos años la ley vasca se ha modificado en cuestiones relacionadas con el tabaco para adecuarlas por un lado a las exigencias de la organización mundial de la salud también de la unión europea y a la legislación básica del estado con el objetivo de proteger la salud de todas las personas

en los trabajadores de hostelería y los menores lo que ha supuesto un paso importante en defensa de la salud pública fruto de estos cambios de los avances normativos de los sucesivos planes de adicciones impulsados desde el gobierno y ayuntamientos

hoy en euskadi son una realidad el creciente papel de la prevención y la promoción de la salud la mejora general

isiltasuna la mejora general del bienestar y de la calidad de vida de las personas la incorporación de nuevas modalidades

y a los nuevos patrones de consumo la equidad y la efectividad de los recursos existenciales y el impulso a la investigación

programas y recursos como el programa de metadona la sala de consumo supervisado

los diferentes programas socio sanitarios el programa de sexo seguro etcétera estrategias eficaces

y daños físicos psíquicos y sociales asociados al consumo de drogas testuingurua kokatzeko ariketa honen amaiera gisa zenbait

hartuko ditut kontuan estas encuestas son fundamentalmente la encuesta euskadi drogas dos mil doce drogas y escuela y la encuesta de salud de la capv del dos mil trece así por aportarles algunos datos

se ha consolidado la tendencia de reducción de algunos indicadores generales de consumo desde el año dos mil

ronda el doce coma dos por ciento sobre todo varones adultos respecto al consumo de fines de semana un once coma tres por ciento de la población se considera bebedora excesiva o de riesgo

y veinticuatro años el porcentaje asciende al veinticinco por ciento ha aumentado la proporción de personas que realizan consumos de riesgo o excesivos de alcohol

en lo referente al tabaco estamos teniendo éxito en la materia y actualmente un veinticinco coma siete por ciento de la población se considera fumadora habitual

esporádica por lo tanto el sesenta y ocho coma ocho por ciento de las personas entre quince y setenta y cuatro años

aunque una tercera parte lo hizo en el pasado desde el dos mil doce se ha consolidado la tendencia de la última década hacia una disminución lenta pero gradual

entre la población más joven en lo referente al cannabis ha descendido significativamente su consumo en los últimos años pero no debemos perder de vista sigue estando entre las regiones y países con mayores de tasas de consumo de la unión europea la mayor prevalencia entre jóvenes entre veinticinco y veinticuatro años es de aproximadamente el dieciséis coma cuatro por ciento y en su mayor parte son más que mujeres en lo referente a otras sustancias ilegales hay un claro descenso su consumo experimental ha descendido del catorce por ciento al ocho por ciento entre el dos mil cuatro y el dos mil doce excepto para la heroína

la cocaína y las anfetaminas son todavía las drogas ilegales más consumidas en euskadi en lo referente a los juegos de azar

un cincuenta y tres por ciento de las personas manifiesta que jugó a alguno de ellos el pasado año la prevalencia de otros juegos de apuestas como máquinas con monedas bingo etcétera es bastante menor en lo referente a la utilización de internet

está conectado durante cinco horas o más al día más del trece coma siete por ciento de la población hacen un uso menor pero intenso entre dos

y después de recordar brevemente la situación actual me gustaría compartir con sus señorías por qué hemos elaborado y solicitado la aprobación de una nueva ley

conocen que el programa legislativo del partido nacionalista vasco preveía aprobar un proyecto de ley sobre adicciones un proyecto completo avanzado y acorde a las necesidades de la sociedad actual si hasta hace relativamente poco todo lo relacionado con las drogas

orden público atención sanitaria o servicios sociales con este nuevo texto legal se pretende su abordaje desde la salud pública enfocando más

y multidimensional desde todos sus ámbitos relacionados el comunitario el familiar el educativo el judicial etcétera una visión integradora

y global de una manera normalizada como departamento de salud hemos trabajado pensando en la salud de las personas que viven en euskadi presentando una propuesta de texto legal

recoge también el resto de aspectos estamos convencidos de que tras haber sido trabajada por este parlamento contamos además con un texto a las creencias preferencias y percepciones del conjunto de la sociedad vasca

nituzke lege hau nola landu dugun azaltzeko quiero destacar que se han tenido en cuenta las referencias internacionales más actuales la oms la estrategia de la unión europea

dos mil trece y se ha consultado también la legislación y normativa tanto del entorno europeo como de las comunidades autónomas y también del ámbito local

como el centro de documentación y estudios de la fundación eguía careaga

cabe señalar que el anteproyecto se envía a todos los departamentos del gobierno vasco a cuarenta y cinco instituciones y entidades

en irekia se ha intentado estructurar el texto sistemáticamente usando una terminología adecuada a la situación actual también es destacable que se ha redactado simultáneamente en euskera y en castellano por lo que la propuesta no era una traducción de un idioma a otro y en todo el proceso ha estado presente

las áreas principales de la nueva ley son promoción de salud

reducción de la oferta inclusión social asistencia sanitaria y socio sanitaria desarrollo y gestión del conocimiento organización institucional y distribución competencial

en ocho títulos dos disposiciones adicionales una disposición transitoria una derogatoria y dos finales el título preliminar

objetivos definiciones y principios generales así como los fundamentos básicos

el título primero se centra en la prevención de las adicciones y drogodependencias y en la promoción de la salud como eje central

la educación para la salud se considera una estrategia básica y se desgranan medidas en relación con todos los ámbitos relacionados se describen medidas tanto de carácter general

a grupos o personas en situación de riesgo me gustaría también destacar el enfoque de implicación y colaboración del conjunto de instituciones de la comunidad

así ayuntamientos mancomunidades centros educativos

de salud servicios sociales etcétera el título segundo hace referencia a la reducción de la oferta en cuanto al tabaco mantiene general la normativa existente y además contempla la equiparación de los dispositivos susceptibles de eliminación de nicotina en relación al alcohol

a los menores de edad expresamente y la venta o suministro de alcohol en todo tipo de instalaciones

los menores de dieciséis años no podrán entrar en establecimientos públicos cerrados que sirvan bebidas alcohólicas salvo que vayan acompañados de sus responsables el proyecto de ley

de más de veinte grados y no se podrá hacer publicidad a menos de cien metros de centros educativos de infantil primaria o secundaria en cuanto al juego y al exceso de

de sensibilización y concienciación para un uso responsable de las tecnologías digitales y sus nuevas aplicaciones el título tercero aborda la asistencia sanitaria

en el título cuarto más adelante el título quinto unifica aspectos que aparecen diseminados

medidas en materia de gestión del conocimiento prevé

por parte de la administración sanitaria social educativa y laboral prevé un impulso a la investigación y la formación en esta materia y contempla

y concreta las responsabilidades y competencias de las diferentes instituciones

y ayuntamientos adecuando la arquitectura institucional y de coordinación como dato de interés la comisión interdepartamental actual pasa a ser una comisión interinstitucional integrada por el gobierno diputaciones

eusko legebiltzarrak egindako lana el texto del proyecto de ley que remitimos en su día ha sido objeto de un intenso análisis por parte de los distintos grupos parlamentarios

todas ellas se han trabajado a lo largo de doce reuniones en la ponencia

hoy culmina un trabajo intenso de más de tres años

como por parte de administraciones entidades y agentes que han hecho aportaciones a la ley integral

no quiero finalizar sin que mis últimas palabras sean de agradecimiento para ustedes y para todas las personas colectivos e instituciones que han trabajado para que euskadi pueda contar hoy con una normativa que sobre todo pretende responder de manera efectiva

actuales y futuras de las personas y de nuestra sociedad en materia de adicciones y que además engarza con la intensa y buena labor que desde hace treinta años se vienen haciendo por parte de las instituciones vascas

señoras y señores consejeros señor lehendakari la ley

es de mil novecientos noventa y ocho y ha sufrido tres modificaciones desde entonces era y es evidente que había que actualizar esta ley de mil novecientos noventa y ocho porque han cambiado muchas cosas desde entonces y porque esa ley prácticamente se centraba

y la ludopatía hoy día hay muchos elementos nuevos todas las nuevas disposiciones sobre el tabaco la aparición de los cigarrillos electrónicos

o las nuevas tecnologías y videojuegos entre otros

oportuno presentar una nueva ley que sustituyera completamente a la anterior en lugar de ir a nuevas modificaciones como se había hecho hasta ahora para

la vieja normativa nosotros presentamos veinticuatro enmiendas de estas veinticuatro enmiendas a lo largo del trabajo realizado en la ponencia y en la comisión se han

siete por lo tanto mantenemos diecisiete algunas de nuestras enmiendas trataban de dar más importancia a las adicciones comportamentales

tal y como hace la unión europea a flexibilizar su uso en determinados lugares a equiparar todas las bebidas alcohólicas independientemente de su graduación alcohólica

en la calle a permitir fumar en las sociedades gastronómicas cuyos socios así lo consideren oportuno

consejos órganos que prevé la ley y sobre todo a limitar y clarificar la distribución de competencias entre el gobierno vasco las diputaciones forales los ayuntamientos

planteadas por upyd se han aceptado por lo demás mantenemos las que no han sido

o transadas asuntos que compartimos del informe compartimos sobre todo lo relacionado con el enfoque de la ley que se abre más a las nuevas

a las drogodependencias la anterior ley estaba muy centrada

a la sociedad compartimos en alto grado el modelo de prevención y promoción de la salud atención sanitaria sociosanitaria y comunitaria

sí se habla más de las adicciones comportamentales y sin sustancias se las cita en muchos artículos de la ley pero

y tratamiento como si se tuviera miedo a admitir reconocer y citar expresamente determinadas adicciones adicciones a la comida

o adicciones al sexo más allá de las clásicas adicciones a los videojuegos y a las nuevas tecnologías asuntos que no compartimos del informe la distinción en muchos artículos de bebidas de más o menos de veinte grados en promoción publicidad exterior eventos deportivos lugares de dispensación

distinción que permanentemente se hace en la ley nos parece profundamente hipócrita que se permita consumir bebidas de menos de veinte grados sin límite y sin embargo se prohíba tomar un chupito de pacharán por poner un ejemplo sencillo

perfectamente ejemplos se permite dispensar bebidas alcohólicas de menos de veinte grados en centros de enseñanza para mayores de dieciocho años universidad

pero no pueden tomarse un chupito de pacharán parece contradictorio parece

hipócrita en las tiendas de las autovías y autopistas se puede vender vino pero no coñac y en las de las carreteras convencionales de todo porque no se citan no tiene demasiado sentido y además se puede hacer publicidad exterior de vinos y cervezas e incluso dentro de estadios deportivos pero no de bebidas con mayor esto también nos parece contradictorio no se pueden vender bebidas alcohólicas en las tiendas entre las veintidós cero horas de la noche

en la ley que finalmente se va a aprobar por otro lado especialmente no nos gusta el título sexto donde se plasma la organización institucional coordinación

todas las instituciones gobierno vasco diputaciones forales ayuntamientos tienen competencias el gobierno vasco tiene que hacer un plan sobre adicciones pero las diputaciones

es decir vamos a tener multitud de planes y para que todo funcione tiene que haber una comisión interinstitucional de coordinación es decir un órgano más sobre los múltiples órganos menores se prevé un órgano de apoyo y asistencia que presta apoyo técnico a la comisión de coordinación y un consejo vasco sobre adicciones

representantes también se dice que las diputaciones y los ayuntamientos podrán crear otros órganos de coordinación consulta asesoramiento y podrán crear más órganos o comisiones especializados en conclusión es una ley necesaria porque la realidad ha cambiado bastante bien enfocada en cuestiones de prevención y asistencia pero que lleva a una cuestión como las adicciones todo el esquema vasco de organización institucional

de crear muchos órganos comisiones subcomisiones consejos y consejillos en fin vamos a abstenernos en relación a esta ley nos habría gustado tener una mejor regulación y una ley menos políticamente correcta en algunos

en todo caso obviamente esperamos que esta ley sirva para tener una sociedad más saludable dicho esto y más allá de nuestra posición en relación a determinadas enmiendas que se han planteado quizás finalmente se voten conjuntamente sí quiero aclarar que vamos a votar a favor de dos enmiendas del partido nacionalista vasco una de ellas transada

me refiero a enmiendas que tienen que ver con el artículo noventa y tres referido a las sanciones y sobre la sustitución de sanciones por cursos y trabajos en beneficios de la comunidad en este punto digamos que había dos transaccionales firmada por el grupo socialista y eh bildu y otra firmada por el partido nacionalista vasco y el partido popular finalmente votaremos a favor de esta segunda porque me parece que es más completa que la primera y en relación también al artículo sesenta y ocho punto

la enmienda planteada por el partido nacionalista vasco nos parece también que es más razonable creo que de ese modo rompemos dos posibles

muchas gracias presidenta señorías consejeros consejeras buenos días a todos bien

seno de la comisión de salud y en la ponencia correspondiente con un trabajo

como ha recordado también el consejero bien nuestro grupo presentó en su momento ciento diez enmiendas

han servido han servido han existido vicisitudes acuerdos convencimientos que nos han llevado a mantener un buen número de enmiendas aunque fundamentalmente en un capítulo en el que no existe una discrepancia de fondo

pretendíamos una búsqueda de una mayor seguridad jurídica pero la cuestión no era fundamental para nosotros en ese sentido

fructífero en una gran medida ha existido un espíritu constructivo en la ponencia aunque nosotros no compartamos algunos aspectos en el texto

pero estaba claro que teníamos que debíamos hacer un esfuerzo parlamentario y un esfuerzo político en este parlamento

muchos años siempre ha existido una actuación unitaria fundamentalmente y una concepción del trabajo para mejorar la salud pública para prevenir la salud de niños y jóvenes para adecuarnos a nuevas realidades en la lucha contra las drogodependencias

efectivamente ya se ha recordado aquí la andadura el iter que ha llevado la materia de la regulación de las drogodependencias a través de sus leyes pero también a través de sus

gracias presidenta han sido muchos los planes al principio

trienales los que abordaban esta materia luego fueron planes quinquenales

como digo desde hace tiempo al unísono generalmente con contadas discrepancias o con desde luego siempre las ha habido pero entendiendo que

la salud de todos nosotros era una

incomodidades pues avanzar en ese camino como decíamos en la comisión el proyecto de ley

un tanto maximalista no queremos decir que fuese

y ahora entendemos que después del trámite de ponencia está más conectado con esa sociedad con esa realidad

los trabajos parlamentarios y para eso sirven los acuerdos

a los proyectos el proyecto de ley arrancaba sin enmiendas de totalidad lo cual es síntoma de que determinados acuerdos era posible

nuestra discrepancia fundamentalmente en algunos aspectos esa discrepancia basada en la legalidad principalmente en el artículo ochenta y tres del proyecto que regula las entidades de personas consumidoras de cannabis

de la misma manera mantenemos enmiendas en lo relativo a la regulación de los denominados cigarrillos electrónicos regulados en los artículos cuarenta y dos al cuarenta y siete del proyecto de ley en lo relativo al

tenemos una consideración menos restrictiva que el texto del proyecto y la seguimos teniendo por eso mantenemos nuestras enmiendas

propusimos una transacción un acuerdo pero no fue aceptado

la equiparación del uso del cigarrillo electrónico al uso del tabaco nos parece excesiva ante las posiciones científicas algunas de las cuales consideran

dispositivos alternativos al tabaco es un debate abierto pero no queríamos vincular tan restrictivamente

al uso del tabaco y hacerlo de una manera homogénea nosotros pensábamos que se podía haber llegado a una transacción que nosotros propusimos pero no ha sido posible por eso sí que mantenemos esas enmiendas

a los clubs sociales de cannabis entendemos que no procede regularlos a través de una norma como la que estudiamos hoy

hay base legal para entender que eso no puede ser así y con la documentación inicial del proyecto tuvimos ocasión de conocer dos informes

que analizaba la procedencia o no de regular la práctica del consumo de estupefacientes como el cannabis en los denominados clubs sociales de cannabis y

esos informes que se manejan son claramente negativas la conclusión

que estudiamos el proyecto de ley de adicciones

se encuadra en una materia cuya regulación corresponde en exclusividad

legislación penal así como de seguridad pública y de productos farmacéuticos eso se corresponde con el artículo ciento cuarenta y nueve punto uno

y veintinueve de ese artículo yo creo que

es un problema que vamos a tener con esta ley desde luego nosotros no vamos a apoyar ese artículo ochenta y tres

de este proyecto de ley es que trata de regular una cuestión que no puede regular ojalá

otras instancias en españa en europa hagan una reflexión sobre esta situación y sobre este tipo de entidades

pero con la actual legislación en la mano una ley autonómica no puede abordar esta regulación

entendemos que debiéramos oponernos a un artículo

por este proyecto de ley por esta ley en definitiva finalmente

como he dicho al principio se refería a distintas consideraciones dentro del título de infracciones y sanciones en que mi grupo buscaba

una homogenización con la ley veintiocho barra dos mil cinco ley conocida como ley antitabaco

y pensábamos que a favor de la seguridad jurídica pues igual homogeneizar este tipo de cuestiones

de la infracción y de la sanción hubiese sido positivo pero vuelvo a decir no es una cuestión fundamental dentro de lo que es el avance que

hemos constatado en el trámite legislativo hemos de resaltar también y eso es verdad y por eso hemos trabajado esta ley con seriedad y con rigor como todas pero especialmente hemos de resaltar también que un buen numero de nuestras enmiendas han procurado

mejoras técnicas mejoras

de rigor legislativo a la hora de mejorar los textos señorías salvo

señalados compartimos los objetivos de esta ley y la necesidad de seguir trabajando entre todos para mejorar la salud de los ciudadanos seguramente dentro de unos años habrá que revisar

sociales sanitarios educativos de nuevos hábitos que nos lleven a reformar yo creo que el camino que ha llevado este parlamento ha sido interesante lo que constatábamos antes de ir analizando esta

planteamientos y de lógicos y entrando un poco en las necesidades en cualquier caso vuelvo a afirmar que ha sido un buen trabajo y que mantenemos nuestras enmiendas y la ordenación de las mismas como ya nos ha propuesto la mesa y que en relación con el resto de artículos de los demás grupos

del señor maneiro muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

hay que reconocer la labor que se viene desarrollando en el marco parlamentario vasco y desde la propia sociedad en general sobre la legislación en materia de prevención asistencia e inserción

como bien ha dicho el consejero esta ley que llegó a este parlamento a tiempo y desde diciembre de dos mil catorce hemos debatido

fácil porque no ha sido fácil pero sí que es verdad que hemos logrado un marco de acuerdo bastante satisfactorio al menos para el grupo socialistas vascos y desde luego quiero agradecer

la primera ley de drogodependencias se aprobó en mil novecientos ochenta y ocho con un enfoque pedagógico y de intervención en términos de prevención y reinserción desde entonces han pasado veintiséis años y ha sido reformada en tres ocasiones la última fue en el dos mil once en época del gobierno socialista el fenómeno social de las drogas y de las adicciones es un fenómeno cambiante y por ello entendemos que es necesario adaptarse a las nuevas realidades y digo a las nuevas realidad y dar repuestas también desde este ámbito legislativo esta nueva ley introduce el concepto de promoción de la salud

los socialistas valoramos muy positivamente pero también es importante y esto creo que hay que decirlo matizar que el fenómeno de consumo

también tiene otra vertiente más social por ello los socialistas vascos presentamos un total de sesenta y cuatro enmiendas con la intención de mejorar el texto original

en el transcurso de la ponencia logramos incorporar cuarenta y nueve que algunas fueron aceptadas en su integridad y otras fueron transadas con los grupos retiramos

y la estrategia europea de materia de lucha contra la droga no hablan solo sobre adicción hablan también sobre droga por eso consideramos oportuno cambiar el título de la ley y finalmente la ley pase a llamarse ley de atención integral en materia de drogas y adicciones

por el propio desarrollo de la ponencia y las modificaciones que se han ido produciendo en el articulado

muy importantes que no figuraban en el anteproyecto tenemos que hablar de atención integral de prevención de daños de reducción de riesgos de drogodependencias y de prevención

de las actuaciones que protejan a terceras personas de perjuicios que puedan causarse tanto por el consumo de drogas y otras sustancias con capacidad adictiva como adicciones comportamentales con una consideración a los y las menores de edad y la juventud así como las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad o exclusión en crear condiciones que favorezcan las actuaciones preventivas adaptadas en el ámbito familiar que se inspiran en el principio de parentabilidad positiva de conciliación de la vida laboral y familiar se hable de corresponsabilidad y por lo tanto ese objetivo debe ser una finalidad de la intervención familiar especialmente cuando se pretende que se impliquen diversos organismos y entidades en concretar más la prevención comunitaria

en el marco de una política global potenciando la mejora de las habilidades personales y la convivencia y en utilizar el medio laboral como mecanismo útil

con riesgo de generar adicciones comportamentales en ese mismo laboral favoreciendo el acceso de las personas

pero preservando su privacidad en lo que se refiere a las bebidas alcohólicas destacar que la ley prohíbe la venta a menores de edad y por eso es muy importante controlar la oferta

de la comunidad científica que señala la necesidad de reducir el acceso de las personas menores y jóvenes al consumo de alcohol y configurar un régimen

en el artículo veintiocho punto uno relativo a la publicidad en materia de bebidas alcohólicas los socialistas hemos incorporado la prohibición de publicidad exterior de bebidas alcohólicas

a las puertas de acceso en los centros educativos de enseñanza infantil

en el artículo treinta y cinco punto cinco referente a la venta en el suministro de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales no destinados al consumo inmediato de bebidas alcohólicas con independencia de su régimen horario no se permite la venta

hasta las siete cero del día siguiente además los socialistas vascos

mucho más allá obligando por ley a estos establecimientos a adoptar medidas especiales de control para evitar la venta de bebidas alcohólicas a las personas menores de dieciocho años

se realizará en una sección concreta estarán colocadas a partir de una altura mínima de metro y medio y con una restricción de superficie de escaparate

el autoservicio puede tener las bebidas detrás de una barra si su venta está controlada por una persona o en una vitrina con llave asimismo donde exista prohibición de suministro y venta de bebidas alcohólicas deberá exhibirse el correspondiente cartel

y esto tampoco lo contemplaba el anteproyecto y nosotros lo hemos incluido en cuanto al consumo de alcohol entendemos la preocupación del gobierno por el botellón y los consumos incontrolados en la vía pública pero también es cierto que el botellón es posible regularlo vía ordenanza municipal

beber alcohol únicamente en los bares terrazas y veladores y hemos considerado que esta medida era excesiva y falta de razón por eso apoyamos la

del punto del artículo donde se especificaba esto en cuanto al consumo de tabaco regulado en el artículo cuarenta punto uno se prohíbe fumar en todos los espacios cerrados y semicerrados de uso público lugares accesibles al público en general o lugares de uso colectivo con independencia de su titularidad pública y privada y hemos logrado consensuar en todos los grupos especificar que no obstante en el caso de espacios cerrados y semicerrados de titularidad privada pero de uso público el consumo del tabaco podrá permitirse expresamente

socias en las normas estatutarias reguladoras de la actividad de la entidad titular que deberá carecer de ánimo de lucro y no incluir entre su objeto social o actividades la comercialización o compraventa de cualquiera de bienes o productos consumibles

también fue muy importante y la ley enmarca la posibilidad de regular

añadido el grupo socialista dentro de la protección de la salud y también de reducción de daños y regularlo como he dicho un reglamento en el caso de las personas mayores de edad que consuman a la vez que se les pida que colaboren con la administración en la prevención y promoción de un consumo responsable

pedimos la supresión del artículo dos punto cuatro donde consideramos inadecuado que las conductas excesivas en la actualidad no conceptualizadas como adicciones comportamentales sean reguladas en la ley se puede convertir en una puerta abierta a muchas intervenciones que desvirtuarían las intervenciones

la número veintiocho en el artículo veintisiete punto uno también consideramos más adecuado regular la promoción de bebidas alcohólicas en ferias de muestras

y que la promoción se realice en espacios diferenciados y separados y no se permita el acceso a las personas menores de edad salvo que vayan acompañadas por personas adultas y que en la entrada

un cartel que advierta de tal prohibición tal y como está redactada la ley

a votar se prohíbe el acceso de los menores de edad a los lugares donde se promocione el consumo de bebidas alcohólicas de más de veinte grados sin incluir ninguna salvedad para ellos para

dicha redacción podría generar confusión y transmitir que el espíritu del legislador es permitir el acceso libre e indiscriminado de los menores a la promoción de vino sidra y cerveza eso hemos interpretado desde el grupo socialista por eso eliminábamos la discriminación

la enmienda número treinta y uno al artículo veintiocho punto tres permite la publicidad de bebidas alcohólicas de menos de veinte grados es decir vino sidra txakolís cervezas y discrimina nuevamente por graduación

no diferencia la graduación puede haber instalaciones y eventos deportivos frecuentados solo por adultos pero la mayoría de los polideportivos

consideramos que dado que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en instalaciones y centros deportivos del mismo modo tendríamos que proteger al menor siguiendo

en materia de publicidad la enmienda número sesenta se refiere a la composición del consejo vasco sobre adicciones hasta la fecha había dos

esta ley reduce a uno y elimina la participación de padres y madres que nosotros hemos considerado que no se debería hacer porque es una parte importante las enmiendas transaccionales que hemos guardado para este debate con eh bildu una es el artículo sesenta y ocho punto unoe referente al ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora en los términos previstos en esta ley

y hemos añadido siempre y cuando dispongan de los recursos necesarios para ejercer dicha potestad en la vigente ley en el artículo cincuenta y cuatro regula las competencias de inspección y sanción y establece que la función de inspección y control recae en las unidades dependientes de la administración general de la comunidad autónoma

el personal que realice las funciones de inspección tendría consideración de agente de la autoridad entendemos que

pues carecería de todo sentido y por último la enmienda de transacción al nuevo artículo veintitrés quedaría redactado de la siguiente manera las sanciones de multa impuestas a personas menores de edad podrán sustituirse de acuerdo con lo establecido en el artículo ochenta y ocho punto cuatro por la inclusión de persona infractora en programas

eliminamos los trabajos en beneficio de la comunidad porque nosotros consideramos mucho más pedagógico y mucho más eficaz

y de esta manera apostar por la prevención eskerrik asko eskerrik asko

aldaketarik proposatu estamos a punto de aprobar una ley que contiene noventa y seis artículos sin duda todos y cada uno de ellos importantes

los artículos que han tenido repercusión y sin duda los que más han tenido han sido los artículos

por eso eh bildu también quiere dejar claro algunos aspectos aplaudimos y apoyamos que la prohibición de fumar

independientemente de dónde se sienten o la localidad que ocupen se sienten en una grada u ocupen una butaca en una zona vip o un palco

eso no ocurría por tanto se termina con ciertos privilegios que no compartíamos ni compartiremos en cuanto a los txokos o sociedades gastronómicas

en esta ponencia ahora serán los propios socios y socias de estos espacios los que decidan y regulen la prohibición o no de fumar en ellos

les concierne autorregularse queremos volver a recordar la supresión del artículo treinta y tres punto tres del texto original a propuesta de eh bildu fuimos el único grupo que enmendó ese artículo gracias al apoyo de parte de la oposición

nos estamos refiriendo al intento de prohibición por parte del gobierno de beber alcohol en la calle si no hubiera sido por nuestra enmienda a partir de la aprobación de esta ley hubiera sido

de la graduación que fuese ni siquiera a las puertas de un establecimiento hostelero siempre y cuando

para imaginar el conflicto que este artículo podría haber supuesto sinceramente creemos que el gobierno tenía intención de acabar con el botellón pero estuvo a punto de crear un problema donde no lo había por tanto gracias a nuestra enmienda como décimos en esta cuestión nada cambia

tiene capacidad y potestad para regularlo a su antojo mediante la elaboración de una ordenanza y en sus manos está el sancionar a cualquier persona que tome una bebida alcohólica en la calle o incluso

en una de nuestras ciudades bukatzeko azaldu eta defendatu nahi ditugu erreserbatu

simplificar siempre he pensado que es un error

no vamos a aprobar lo que vengo oyendo que se va diciendo simplificadamente la ley de adicciones

y no estoy hablando de aquello que cantaba sabina de que lo bueno de los años es que cura las heridas y lo malo de los besos es que crean adicción

todos sabemos que hablamos de adicciones que anulan la libertad individual crean enfermos y generan conflictos familiares y sociales que no pueden dejar de abordarse por los poderes públicos que más que nunca se deben poner en el papel de prevenir y ayudar para lograr una sociedad que sin perder su libertad sea más equilibrada y estamos hablando de libertad

filosofo positivista que dijo que toda persona es libre de hacer lo que quiere

y aprobar la ley que hoy vamos a aprobar significa que hemos legislado aplicando ese aforismo y esa es una de las razones por las que el grupo que yo ahora represento se siente cómodo al aprobarla por otro lado y entendiendo como dijo nehru

el grupo eaj pnv ha trabajado conjuntamente con el gobierno vasco y el resto de grupos parlamentarios

lleno de responsabilidad tanto de la responsabilidad de respetar la libertad de todas y todos los que formamos la sociedad vasca como la de configurarnos en un poder legislativo

que permita prevenir riesgos objetivos y que promueva sobre todo soluciones equilibradas a los diferentes conflictos que se plantean ante consumos que puedan crear adicción todo ello además

de todas y cada una de ellas y para trabajar la prevención el mejor métodopara evitar el sanar

pero que para acudir a ella se requiere previamente sufrir un daño que es precisamente lo que esta ley pretende evitar

del consumo de sustancias objetivamente dañinas y ante sus posibles consecuencias a pesar de nuestras diferencias hemos sido capaces de pactar una ley así con el grupo socialista se han transado treinta y seis enmiendas se han aceptado trece con bildu

con el grupo popular transaccionadas veinticuatro y aceptadas quince y por último con upyd transaccionadas cinco

nuestro grupo conjuntamente con el grupo popular sostenemos una enmienda de transacción para resolver la redacción original del artículo noventa y tres en la que sin quebrar

se sostiene la posibilidad de que la autoridad competente en materia de sanciones pueda sustituir la multa por trabajos en beneficio de la comunidad o en su caso con la inclusión de la persona infractora en programas preventivos de carácter formativo esta última parte también la sostiene la enmienda pactada entre el grupo socialista y bildu luego la única

por trabajos en favor de la comunidad sin afectar a la sustancia de la ley no es baladí el debate respecto a los modos de abordar la pena sentenciada

si es socialmente bien admitida la pena de actividades para la comunidad como alternativa a la pena más clásica y casposa de la multa

desde la coeducación y desde la corresponsabilidad hay que ofertar otras posibilidades a los penados y a los penadores

denle más oportunidades que también las actividades en favor de todos son formativas de un espíritu solidario el otro asunto que requiere de un posicionamiento

en el que tras describir las competencias municipales en el ámbito de esta ley

que se aplicará siempre y cuando dispongan de los recursos necesarios para ejercer tal potestad

quién decide si disponen de los recursos necesarios el ayuntamiento el gobierno la diputación y todo esto

y hoy mismo que los ayuntamientos ya son mayorcitos para ejercer sus potestades sobre todo para regular el consumo de alcohol en la calle pues si son mayorcitos lo son

además el texto propuesto por el gobierno y aceptado por nuestro grupo ya añade que tal potestad se puede ejercer individual o de manera mancomunada ahí tienen sumando con otros la posibilidad

no entendemos la enmienda ni la compartimos los ayuntamientos son responsables de la materia y no se puede ser ayuntamiento medio pensionista que sí o no según qué cosa y lo desagradable también entra en sus competencias porque la ley y su aplicación

y además seguridad jurídica seguridad no garantizada con la enmienda que han presentado ambos temas nos ha anunciado hoy el señor maneiro que nos va a apoyar nuestra postura lo cual es de agradecer respecto

en las puertas de las hostelerías ha faltado señora blanco que diga una cosa nosotros buscamos una transacción entre la propuesta del gobierno y su enmienda que era efectivamente poder beber en las puertas

no venga con uno y otro hubo una posición intermedia no pasa nada no puedo dejar de citar brevemente el acoso sufrido esta semana nuestra

que en su momento incentivó ese debate aquí ahora se esté absteniendo pero bueno nuestra posición en ese tema es simple sin más valoraciones ni siquiera la del acoso que en cualquier caso es legitimo aunque cansino

es la del departamento de salud del gobierno vasco y es la de la organización mundial de la salud que nadie dudará de estos organismos que en este tema son una referencia tampoco puedo dejar de hacer una referencia a la regularización de los clubs de cannabis que se ha realizado según lo aprobado esta misma legislatura por la ponencia correspondiente

este es su exponente aceptar lo que hay como fruto del libre albedrio y regularlo con responsabilidad y apelando a la responsabilidad que exige su consumo para con cada uno y para con el resto de la sociedad beste guztiaz ez naiz luzatuko soilik

y además de quedarme con la satisfacción del trabajo hecho y del consenso logrado creo que también se debe destacar que con una ley como la que hoy vamos a aprobar supone en conclusión un paso más en el avance hacia una sociedad que sin perder un ápice de su libertad

lo que algunos llaman tradiciones por lograr en el ámbito de la salud pública un mayor equilibrio entre todas las fuerzas que contrapesan en la sociedad esta ley

una sociedad más consciente de sus propios problemas ante lo que solo pudieran parecer rutinarios consumos esta ley es dotar de mayor relevancia social a la salud

es entender entre todos que cediendo parte de nuestros modos podemos avanzar hacia una sociedad más equilibrada más saludable más responsable más solidaria

y seguramente más feliz en definitiva esta ley se ha construido en el juego entre la sensatez y el albedrio porque como dijo elbert hubbard la responsabilidad es el precio de la libertad muchas gracias

tellería en su intervención y básicamente bajo para contestarle y al señor maneiro también una cuestión que antes nos ha quedado por decirle respecto a la enmienda transaccional que tenemos al artículo noventa y tres señor maneiro no es que sea más completa la que presenta la transaccional del partido popular y el pnv es que

es diferente y es cierto que la diferencia sustancial también la ha nombrado el señor tellería son precisamente los trabajos a la comunidad sí se las da a elegir se les da a elegir a los menores de edad

bien o a incluirse en programas formativos que es lo que proponíamos el partido socialista y eh bildu o bien a hacer trabajos a la comunidad

oportuno utilizar en este caso medidas pedagógicas que no estigmatizantes que así las consideramos

en cuanto al beber o no beber

es cierto tengo que admitirlo y así es en la ponencia intentaron ustedes llegar a un acuerdo con nosotros con lo cual demuestra que seguramente tampoco estarían muy de acuerdo con el texto original cuando intentaban cambiar el texto original

complicado llegar a un acuerdo en ese aspecto porque la única manera de hacerlo era encontrar excepciones excepcionalizar

muy difícil encontrar un texto con el que nos hubiéramos puesto de acuerdo y no hemos sido los únicos porque también han intentado lograr acuerdos con enmiendas vivas con otros grupos que no tenían enmendado ese artículo por lo tanto el esfuerzo sé que ha sido importante por su parte

ordenanzas si no son tan mayores según nosotras según el grupo socialista y nosotras para poder sancionar estamos hablando de dos cosas muy diferentes en la ley

que son los ayuntamientos los responsables de inspeccionar y de sancionar

dejación de manera intencionada en este caso de sus deberes por eso decíamos que siempre y cuando tengan

pues que lo hagan pero si no lo tienen también tenemos que tener en cuenta y otra cosa muy diferente son las ordenanzas que puedan hacer o no puedan hacer con el tema del alcohol

hay un ejemplo muy claro en este caso el tema de las lonjas

los chavales y chavalas en nuestras ciudades y en nuestros municipios hay ayuntamientos y hay lugares donde

y son absolutamente capaces tienen la capacidad de poner las herramientas

puede ser una ordenanza puede ser otro tipo de medidas puede ser un manual de buenas prácticas

es decir hay muchas maneras de hacerlo con lo cual la diferencia entre una cosa y otra es sustancial sin más vamos a mantener

evidentemente las dos enmiendas que tenemos transaccionadas con el grupo socialista a pesar de que creemos que no se van a llegar a votar por el apoyo en este caso del señor maneiro

muchas gracias muy rápido podría hablar desde el escaño pero ahí me siento más incomodo prefiero

en primer lugar la pena de trabajos en favor de la sociedad nunca será estigmatizante cuando

prevé que el penado acepte esa pena luego

no se le aplicará es decir la ley favorece esa posibilidad de trabajos en favor de la comunidad y al mismo tiempo le dice al penado oiga elija usted si quiere esto la multa o un curso formativo hombre cuantas más posibilidades demos mejor estamos trabajando

y por tanto creo que tiene que ser lo que tiña todo el texto de esta ley respecto a lo del alcohol en la calle

no se parapete en la complejidad de la gestión no se parapete el texto se lo dimos

le pareció mejor decir a la opinión pública que usted defendía la tradición del poteo

no hemos roto la tradición del poteo que por cierto en mi pueblo desde luego el poteo toda la vida ha sido de bar en bar por dentro y si solo teníamos un bar de un lado de la barra al otro lado de la barra pero bueno

nos ofrecimos a buscar un pacto que no quiere decir que no nos guste el texto del gobierno que puede que no nos guste pero en todo lo que hemos transaccionado qué ha sido que no nos gustaba el texto del gobierno o que hemos buscado un pacto buscar un pacto no es que no me guste el texto del gobierno

y respecto a los ayuntamientos vuelvo hablar de libertad y responsabilidad

estamos poniendo en duda su enmienda que deja en un no sé

si pueden hacerlo pues que lo hagan y si no pueden hacerlo que se mancomunen que la propia ley se lo favorece es decir no ponemos en duda la capacidad de la buena voluntad de los ayuntamientos y sin más creyendo que

señora presidenta la ciento diecisiete ciento veinte ciento veintitrés y ciento veinticuatro

ciento veinte ciento veintitrés y ciento veinticuatro y el resto

bai barrio jauna por favor veintiocho aparte

muchas gracias presidenta en julio del año pasado cuando defendí nuestra enmienda de totalidad al proyecto de ley municipal presentado por el gobierno vasco única enmienda de totalidad que se presentó expresé

fundamental por la que presentamos aquella enmienda porque esta ley no aporta nada relevante y las leyes deben ser y servir para transformar la realidad

no para dejar todo básicamente como está y esta ley en concreto no aporta nada relevante decía y además consolida el entramado institucional vasco que nosotros queremos cambiar

edukitzeko y añadía que presentamos la enmienda de totalidad porque el gobierno vasco pretende con este proyecto de ley expresamente se decía culminar el proceso de articulación entre los tres niveles institucionales de euskadi y completar el edificio institucional vasco en lugar de

nosotros defendíamos defendemos y seguiremos defendiendo porque el gobierno vasco subraya que el proyecto de ley respeta escrupulosamente la singular posición que asumen los territorios históricos en el entramado institucional en lugar de subrayar la necesidad de avanzar en su modernización simplificación

más pronto que tarde de una arquitectura institucional acorde a nuestras necesidades y porque este proyecto de ley decía en definitiva pretende consolidar

ineficiente y absurdo entramado institucional mientras que upyd considera que su reforma y su modernización es urgente e indispensable

presentar una enmienda de totalidad a un proyecto de ley que no cambia ni mejora nada o que se queda muy lejos de lo que debería

no es boicotear u obstaculizar nada es simplemente luchar y defender nuestras ideas también en sede parlamentaria los verdaderos boicoteadores decía en aquella ocasión son los que han sido incapaces de traer una ley municipal decente al parlamento vasco

o los que simplemente entienden la política como mantenimiento de las estructuras antiguas y reparto de cargos en lugar de entenderla como lo que realmente debería ser

y renovación en julio le decíamos al gobierno vasco que esta no es la ley que necesita la sociedad vasca euskadi necesita una distribución competencial clara entre las distintas instituciones existentes y esta ley municipal no cumple con la labor esperada finalmente se queda muy corta y

una ley municipal que fije clara y definitivamente las competencias a asumir por las corporaciones locales una ley municipal que garantice realmente la autosuficiencia financiera de las entidades locales una ley municipal para reformar y modernizar la estructura

una ley municipal para situar a los municipios en el lugar que les corresponde como institución más cercana a los ciudadanos que puede realizar un papel esencial en la satisfacción de sus necesidades más perentorias una ley municipal que impulse también la fusión de los municipios más reducidos y una ley municipal que garantice la participación ciudadana y la máxima transparencia sin embargo ni aquel proyecto ni el dictamen que hoy se nos presenta supone ningún avance relevante ni cambia nada sustancial y sobre todo consolida

es como digo una oportunidad perdida y esta es la razón esencial de nuestro voto en contra de este dictamen y en contra de esta ley

reconozco reconozco que es arto difícil que una ley municipal

de entramado que tiene euskadi las medidas a tomar deberían ser integrales habría que promover antes otro tipo de reformas legales

enmiendas parciales es imposible modificar lo sustancial de esta ley y promover de ese modo la reforma del entramado institucional vasco

es lo que tenemos a día de hoy pero nosotros con esa posición política de presentar aquella enmienda de totalidad de presentar también las enmiendas parciales

y nuestra posición de finalmente hoy votar en contra de esta ley lo que queremos decir es que no estamos de acuerdo con este entramado y que por lo tanto habría que impulsar antes otro tipo de reformas más profundas más radicales en el buen sentido del término y más modernas que pudieran como digo hacer que tengamos cuanto antes otra arquitectura institucional

en este parlamento que una comunidad autónoma como euskadi de apenas dos millónes de habitantes disponga de cuatro parlamentos cuatro gobiernos tres haciendas tres políticas fiscales o doscientos cincuenta y uno municipios cuántas veces lo he dicho

reconozco que es una posición minoritaria en este parlamento pero ustedes también deberán reconocer que este discurso en relación a estas cuestiones es un discurso

y que en todo caso esperamos que pueda servir al menos para plantear

plantea efectivamente decía una comunidad autónoma con cuatro parlamentos cuatro gobiernos tres haciendas tres políticas fiscaleso doscientos cincuenta y uno municipios una comunidad autónoma de apenas dos millónes de habitantes esto no tiene ningún sentido y decía que tiene doscientos cincuenta y uno municipios y por cierto

el noventa y cuatro por ciento de los municipios alaveses y las dos terceras partes de los vizcaínos y guipuzcoanos

dos municipios vascos tienen menos de cien habitantes veintiuno están entre los ciento uno y los doscientos cincuenta residentes setenta y ocho entre doscientos cincuenta y uno y mil habitantes cuarenta y siete no llegan a los dos mil y treinta y seis más se sitúan entre los dos mil uno

habitantes solo sesenta y siete ayuntamientos vascos de los doscientos cincuenta y uno que existen sobrepasan los cinco mil habitantes hay más

habitantes el número mínimo que el consejo de europa considera necesario para prestar servicios adecuados y solo veintiuno

habitantes la magnitud que diversos estudios establecen como

para la prestación de servicios adecuados a la sociedad el tamaño y la población de los municipios se ha demostrado que es una fuente más de desigualdad para los ciudadanos que dependiendo de dónde residen disponen y disfrutan de mayores y mejores

este es un hecho perfectamente comprobado por lo tanto habría también que llevar a cabo esa reconsideración seria del mapa municipal vasco en la línea de lo que se ha hecho en muchos países europeos esto se ha hecho

en alemania en dinamarca en bélgica en holanda en grecia o en suecia

una fusión de determinadas instituciones para prestar mejores servicios públicos que al fin y al cabo ese es el objetivo de cualquier partido político y de cualquier institución pero el proyecto de ley municipal presentada por el gobierno descartaba la fusión de municipios y desaprovechaba una oportunidad para iniciar ese proceso y el dictamen que se nos presenta sigue en la misma línea conservadora además no se actualizan las singularidades históricas

a varias entidades es decir lejos de ordenar el entramado institucional se parchea

desmesurada el proyecto de ley señalaba determinados objetivos que podríamos compartir pero lo cierto es que

termina cumpliendo y lo cierto es que señala esos objetivos pero no termina de alcanzarlos se consolidan las todopoderosas diputaciones forales no se lleva a cabo una clarificación suficiente de las competencias municipales no se garantiza la autonomía municipal y no se garantiza la igualdad de los ciudadanos vascos independientemente del municipio donde resida es por lo tanto un texto profundamente conservador

insisto entiendo que la posición política de upyd es radical en el sentido de que va a la raíz de los problemas entiendo que todo esto que nosotros planteamos no se puede resolver con la aprobación de una ley municipal pero hay que ponerlo encima de la mesa y volvemos a reclamar una reforma profunda del entramado institucional un entramado que sea más útil y esté al servicio de los ciudadanos vascos estas son las razones por las cuales nosotros mantenemos nuestras enmiendas y votaremos en contra

dela hoy volvemos a fijar la posición del grupo popular

proyecto de ley municipal que por cierto también se le ha cambiado el nombre va a ser la ley

locales tenemos que decir que no es una ley cualquiera es una ley esencial para la vertebración o culminar mejor dicho la vertebración institucional y

de euskadi en ese sentido podemos decir que cierra el entramado institucional en la cav es la gran asignatura pendiente en treinta años de desarrollo de nuestra autonomía

con retraso el proyecto de ley mejor dicho llegó con retraso respecto a las previsiones del propio calendario legislativo en el propio calendario legislativo se señalaba que llegaba el primer semestre de dos mil catorce y llegó el doce de noviembre de dos mil catorce nuestra posición la posición del partido popular

foral de álava formulamos alegaciones al texto en ese momento

cuando ya llegó como digo con retraso el proyecto de ley al parlamento vasco

no presentó una enmienda a la totalidad sí que es cierto que debatimos una enmienda a la totalidad de upyd que fue rechazada también en esta cámara pero quitó para que este grupo presentara ciento ochenta y dos enmiendas parciales entendiendo que la ley adolecía o tenía cuestiones que había que subsanar y que corregir y otras que mejorar me voy a referir brevemente al pacto entre

sí que ha chocado que no se haya buscado el consenso

nos ha chocado que se haya dejado fuera al partido

siendo el socio preferente y siendo la ley según el gobierno una de las leyes más importantes de esta legislatura este acuerdo

hay que recordar que además habilitamos enero como mes hábil para reunir la ponencia y no se reunió hasta finales mismos de ese mes el acuerdo el cambio de cromos mejor dicho entre el partido nacionalista y eh bildu eh bildu y el partido nacionalista

estuvo hecho y ese cambio de cromos entrañaba o conllevaba mejor dicho la entrada también de eh bildu a eudel

el hambre con las ganas de comer porque el partido nacionalista obviamente tenía una urgencia de sacar

importantes por cierto una ley que lleva pendiente más de treinta años

el partido nacionalista vasco que ha estado de forma ininterrumpida en el gobierno vasco salvo el periodo de la legislatura pasada cuatro años como digo

condicionado por las urgencias de ambos partidos y fruto de ese acuerdo va a salir hoy la ley municipal

que va a ser aprobada hoy por estos dos partidos creemos que no se ha aprovechado debidamente la singularidad de nuestras instituciones

los municipios y las propias entidades locales en lo que tiene que ver algunas específicas como los concejos y las cuadrillas no se ha tenido debidamente en cuenta esta

también nos ha chocado que algunos partidos que reivindican constantemente que precisamente además son los dos que han pactado esta ley

en cuenta la peculiaridad de nuestro entramado institucional para precisamente y viendo que llegamos tarde

una de las leyes más ambiciosas y más novedosa y desde luego a la altura de las circunstancias por eso décimos que este gobierno

ambición bastante importante en esta materia creemos que se ha perdido una oportunidad en la clarificación competencial

y la financiación de las distintas instituciones no se ha incidido debidamente y eso que esta cuestión ha sido tratada específicamente en este parlamento

el tema de las duplicidades creemos que se tenía que haber incidido en la eliminación de duplicidades entre las distintas instituciones y finalmente en la materia de transparencia

creemos que podíamos haber ido muchísimo más allá y habernos situado también en la vanguardia en algunas de estas cuestiones el partido popular en ese sentido ha mantenido

con la materia de transparencia porque creemos que está ley se va a quedar absolutamente corta y se le ha dado un barniz de transparencia

creemos que se podía haber ido mucho más allá en esta cuestión sí planteábamos y mantenemos las enmiendas que tienen que ver con la comisión de gobiernos locales aprovecho para decir que hemos mantenido todas aquellas enmiendas que no han sido admitidas a lo largo de la tramitación en el debate en la ponencia otra cuestión que nos parece capital en relación al consejo vasco de finanzas públicas que también tiene que ver con la

esos miembros los miembros sean designados por las juntas generales de los territorios históricos y no por el lehendakari a propuesta de eudel creemos que

en las decisiones políticas en definitiva se ha perdido una oportunidad de hacer una ley a la altura de las circunstancias como decía de nuestras especificidades

de forma real a las necesidades

haber sido más ambiciosos en toda la información detallada que tiene que ver con

los organismos autónomos de las entidades públicas vinculadas o dependientes fundaciones públicas consorcios sociedades mercantiles

información de campañas de publicidad institucional composición de las mesas de contratación los datos sobre el volumen presupuestado sobre los contratos

de las ayudas por lo tanto en materia de transparencia podemos decir claramente que el acuerdo entre bildu

un acuerdo de profundidad y de calado en materia de transparencia que como digo teníamos una oportunidad de haber llegado ahí y voy finalizando señora presidenta

en el tema del euskera sí nos preocupa que se hace

puede ser la normativa actualmente existente y se introduce en el texto mucha confusión en relación a que el euskera y el castellano son las dos lenguas oficiales y garantizar el ejercicio efectivo de los ciudadanos a escoger la lengua oficial que deseen

haya sido entre dos fuerzas nacionalistas y por lo tanto se ha escorado

hacía las posiciones que estos partidos mantienen en materia lingüística sí nos preocupa una cuestión concreta que se haya introducido

la posibilidad de introducir cláusulas para que los servicios públicos prestados por terceros los ciudadanos sean atendidos en la lengua oficial que elijan y el servicio se preste en condiciones lingüísticas equivalentes a las que sean exigibles a la administración titular del servicio

presidenta pero sí me voy a detener en una cuestión que creo que además es una verdadera trampa para los ayuntamientos que es el tema de las ayudas de emergencia social

a los ayuntamientos en un determinado porcentaje diferenciado también en relación al tamaño de los municipios

otra cosa distinta es que los ayuntamientos en este momento algunos y en virtud de que las necesidades no son cubiertas con la consignación de las ayudas de emergencia social que tiene previsto el gobierno vasco sistemáticamente en sus presupuestos y que no llega deciden complementar esas ayudas de emergencia social

con la regulación que se va a aprobar hoy se establece una obligación adicional de pago a los ayuntamientos que ahora no tienen que es bastante preocupante y ya sí que acabo señora presidenta

falta de ambición se ha ido claramente a cubrir el expediente y ahí se han encontrado dos partidos que tenían unas necesidades muy claras de tipo

y desde luego el grupo popular después de treinta años señorías esperaba algo más sobre todo teniendo en cuenta municipal no era una ley cualquiera en ese sentido mantenemos nuestras enmiendas como he señalado y también como creemos que el texto acordado o el acuerdo

al final empeora el texto original en algunas cuestiones hemos presentado

del proyecto de ley obviamente en aquellas cuestiones que estábamos de acuerdo inicialmente besterik gabe

que debiera ser destacado en la historia política de euskadi porque por fin aunque sea con un retraso de treinta y tres años

propia porque por fin vamos a completar la base legal de las instituciones que vertebran nuestro país definiendo el marco de actuación de los municipios como hace ya décadas

pero siento decirlo créame que los socialistas lo lamentamos va a ser una mala ley municipal una ley poco respetuosa con el ámbito local

que municipalista es todo un síntoma que el texto haya perdido su denominación originaria

en vez de ley municipal a lo mejor el nuevo nombre es más preciso pero la desaparición del adjetivo municipal no es en este caso precisamente porque señorías no estamos hablando de adjetivos sino de contenidos por eso mi grupo que es sin duda el que más ha peleado en este país durante décadas

no va a respaldar con su voto esta ley por insuficiente porque pone más énfasis nacer salvaguardas de las competencias de los territorios históricos

y se habla más de lo foral que de lo municipal en muchas ocasiones porque por mucho que se diga señores del pnv y señores de bildu

del concierto institucional vasco el proyecto ya era deficiente en origen

en su tramitación parlamentaria por eso el grupo socialista no presentó una enmienda de totalidad y sí una batería de enmiendas parciales

más de dieciséis meses después el proyecto es verdad que ha tenido alguna mejora parcial pero también ha sufrido empeoramientos en algún aspecto y sobre todo mantiene su sesgo foralista y en el fondo no nos engañemos antimunicipal algo que no me sorprende en el pnv

en aprobar esta ley pero que llama la atención en una formación como bildu que ha tragado con este enfoque de la ley a cambio por cierto de concesiones nada sustanciales salvo la entrada por cierto con mucho retraso en los órganos directivos de eudel

o debiera de tratarse se garantiza definiendo con claridad el marco de actuación que corresponde a este nivel institucional y dotando a los ayuntamientos de los recursos adecuados y suficientes para desarrollar esas competencias pero no por delegación o por concesión graciosa de otras administraciones

de igual a igual ese debiera de ser el objeto troncal de esta ley

pero no ha sido así después de llenarse la boca con el derecho a decidir los partidos nacionalistas van a dejar a los municipios vascos sin capacidad de decidir sobre casi nada con una autonomía recortada y controlada como hasta ahora

y voy a reiterar brevemente los motivos que fundamentan la postura del grupo socialista en lo que se refiere al marco competencial consideramos que el texto es claramente insuficiente debiera de precisarse mejor que las competencias propias tasadas en la ley

y las potestades que le acompañan como defendemos en nuestras enmiendas y que la atribución de nuevas competencias a los municipios

contando con su aceptación previa y acompañada de los recursos económicos necesarios respecto al tratamiento del euskera consideramos que tanto este como el castellano son lenguas oficiales por lo que tienen que ser lenguas de uso de trabajo y de relación con la ciudadanía y eso había que haberlo plasmado

y además intencionadas nosotros defendemos que cualquier ciudadano se pueda relacionar con la administración también con su ayuntamiento en el idioma oficial que elija por igual y tal y como queda la ley esto no se garantiza y deja además al arbitrio de los ayuntamientos que estos dispongan o no de servicios de atención en euskera y en castellano estamos en desacuerdo con que al consejo vasco de políticas públicas locales órgano que reúne todos los niveles institucionales para coordinar las políticas locales

que puedan afectar a las competencias municipales algo verdaderamente sorprendente porque curiosamente el consejo sí puede actuar ante el ejercicio de competencias de las instituciones comunes que interfieran en el ámbito propio de los municipios pero no se sabe por qué misterios se le escamotea la posibilidad de hacerlo

vulnerar derechos de los municipios debe de ser el pase foral aplicado en el seno de la comunidad autónoma vasca lo mismo sucede con la comisión de gobiernos locales de euskadi

ante iniciativas del gobierno o del parlamento vasco que puedan menoscabar

sin embargo se deja fuera de su ámbito de actuación también las iniciativas de las diputaciones y de las juntas generales como si estuvieran por encima del bien y del mal pero el punto de mayor desacuerdo es el referido a la financiación municipal en el proyecto la participación de los municipios en los tributos concertados

y de acuerdo a criterios objetivos y comunes para los tres territorios históricos en absoluto por mucho que bildu quiera vender como gran avance lo que ya estaba en el texto original

el problema es que sí tienen voz y voto pero no tienen capacidad alguna de decisión no están en absoluto en un plano de igualdad por mucho que se diga y la redacción del artículo ciento dieciocho del proyecto lo dice muy claramente no dice que esos recursos se repartirán

institucionales acuerden soberanamente en el consejo de finanzas no eso no lo dice el proyecto de ley lo que dice es que la determinación de los recursos que le corresponde a los municipios

es competencia de sus órganos forales los cuales la ejercitarán libremente

extemporánea de alabanza a lo foral en una ley municipal se hace la concesión de que en su caso el reparto se pueda ajustar a los criterios que acuerde el consejo vasco de finanzas o no sin el voto de representación autonómica por cierto

para los municipios carecen de fuerza vinculante ya que solo tienen carácter

de política fiscal dónde está por tanto la capacidad de decisión de los ayuntamientos en el reparto de tributos si lo que acuerden no tiene fuerza vinculante solo carácter de recomendación

el remate que proclama que los territorios históricos se podrán apartar de dichos criterios si la diputación de turno

cómo se puede sostener con una cierta solvencia que con esta regulación se respeta la autonomía de los ayuntamientos y su interlocución en pie de igualdad

no existe se ha camuflado pero no existe estamos como estábamos eso sí

el estatuto es verdad que atribuye a los territorios históricos la facultad de regular y recaudar los impuestos concertados es verdad pero no les concede

ni la potestad de distribuirlos a su antojo a los municipios eso es una interpretación sui géneris del partido nacionalista vasco no algo que se recoja en ninguna legal hubiéramos aceptado por ejemplo que en la ley del concierto económico se dijera algo similar respecto a la administración del estado que podrían apartarse

verdad que hubiera supuesto un escándalo político mayúsculo pues eso es lo que ustedes acaban de hacer

y por todo esto por coherencia municipalista los socialistas no vamos a dar nuestro voto positivo a un proyecto de ley que tiene en tan baja consideración la autonomía

de los ayuntamientos de euskadi vamos a votar en consecuencia a favor de las enmiendas presentadas y mantenidas por el partido socialista y vamos a oponernos
a las de los demás grupos y al texto de la ley muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

arloan gizarte zerbitzuaren arloan la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local una ley hecha por el partido que más casos de corrupción tiene en toda europa

pensaba el ladrón que todos eran de su condición esa ley pretende recortar en materia de servicios sociales la competencia municipal simplemente a la mera evaluación

privatizar servicios públicos intervenir a los ayuntamientos es un ataque frontal contra la autonomía local pero en el ámbito de los servicios sociales

pues bien en la ley que hoy vamos a aprobar se establece la competencia municipal para ordenar planificar y gestionar los servicios sociales es decir un dique de contención contra los recortes que vienen de madrid es decir poner en valor y apuntalar la labor que vienen haciendo los servicios sociales de base

que están viviendo muchas personas en nuestro país nada mejor que un ejemplo para ver para qué sirve esta ley para apuntalar los servicios sociales que se están dando en estos momentos desde

locales otro ejemplo otro de los ámbitos materiales con posibilidad de desarrollar competencias exclusivas por los municipios importante en cualquier coyuntura

esta ley recoge también en el artículo diecisiete la competencia propia de los ayuntamientos en materia de desarrollo local económico y social y planes locales de empleo por qué digo que es importante pues para evitar noticias como esta noticias que se daban hace dos semanas

alcaldes y concejales de durangaldea han denunciado la injerencia que representa el programa de reactivación comarcal que la diputación va a poner en marcha en durangaldea para impulsar setenta y cinco proyectos

este es un ejemplo que queremos evitar esto sí que es foralismo mal entendido señor pastor mejor dicho provincionalismo muy mal entendido viene

qué planes de empleo tenemos que llevar a cabo cuando son los ayuntamientos y las mancomunidades las que mejor conocen cuál es la realidad social

de ese lugar pues bien saben quién ostenta

el área de empleo en la diputación de bizkaia el partido socialista de euskadi

poco menos que nos plegamos a una visión foralista del país que tiene el partido nacionalista vasco pues bien señor pastor y señora mendia le pueden decir ustedes a la señora laespada que es la diputada de empleo y al señor garcía el director de empleo antiguo alcalde de barakaldo porque parece que a ustedes no les gustan las diputaciones a no ser que sea para ocupar un asiento allí les pueden decir

es una competencia propia de los ayuntamientos les pueden decir que vayan a sacarse la foto a otro lugar

que era necesario a una buena ley para las entidades locales una ley que cuenta con el apoyo que va a contar con el apoyo de las formaciones que ostentan el ochenta por ciento de las alcaldías

no hayan querido sumarse a este acuerdo para darle mayor pluralidad podemos entender en el caso del partido popular ya que su modo de país y el de euskal herria bildu son totalmente antagónicos

que euskal herria bildu entraba en la negociación se apartaran de la manera sectaria que vienen haciéndolo durante toda esta legislatura hay una canción de un grupo

ateri denean euritaz ariko gara ahí siguen ustedes encharcados y enfangados en lluvias antiguas

lo que nos ha costado mucho más entender es la actitud del partido socialista que desde el momento que ha visto que euskal herria bildu entraba en el debate se ha apartado querían vender ellos la ley municipal querían apropiarse de la medalla de la ley municipal en exclusiva y no la quería compartir con nadie más

no fueron capaces en la anterior legislatura cuando gobernaban

para aprobar una ley municipal parece que no compartían el proyecto

de ustedes y ahora no son capaces de llegar con euskal herria bildu ni con el partido nacionalista vasco tampoco a un acuerdo para una ley de entidades locales ustedes en este tema son
como aquel que va por la autopista en dirección contraria y piensa que el resto es el que se ha equivocado eskerrik asko maeztu jauna

defendió e hizo valer nuestros derechos históricos y nuestra singularidad foral

que algunos quieren eliminar y otros parecen poner en tela de juicio y precisamente gracias a ello hoy podemos aprobar esta ley que completa la arquitectura institucional vasca y constituye junto con el estatuto y la denominada lth

configurando un modelo de régimen local propio que nada tiene que ver con el de los municipios del régimen común y que les va a dar estabilidad y seguridad jurídica tres han sido los parámetros básicos para su elaboración y tramitación en primer lugar algo que pudiera parecer obvio que es el respeto del marco jurídico institucional vigente en segundo lugar

del sistema institucional vasco que a diferencia de los anteriores proyectos se ha logrado un importante consenso además entre las distintas instituciones las distintas sensibilidades políticas

bildu gipuzkoa y pp araba y la asociación de municipios vascos eudel y en tercer lugar contar con el mayor respaldo posible

enmiendas de todos los grupos parlamentarios únicamente entre comillas tendrá el apoyo del partido nacionalista vasco y de eh bildu algunos parece que tratan de restar legitimidad a este acuerdo lo cual es injusto y no se corresponde con la realidad ya que es un acuerdo de gran legitimidad

y a los partidos que gobiernan en ciento noventa y siete de los doscientos cincuenta y uno municipios de esta comunidad autónoma

porque regula dos aspectos básicos de la autonomía local las competencias y su financiación

a nivel estatal fruto de esta ley podemos afirmar que nuestros ayuntamientos van a ser verdaderos poderes locales y no unos meros prestadores de servicios se les va a dotar también de visibilidad institucional en el sistema de poderes públicos vascos

importantes mecanismos de cooperación interinstitucional el consejo de políticas públicas locales un órgano de puesta en común entre las administraciones de los tres niveles de la comunidad autónoma

institucional y la comisión de gobiernos locales órgano pionero de alerta temprana en defensa de la autonomía municipal

esta ley va a permitir al municipio vasco un amplio margen de actuación como mínimo el que venía desarrollando hasta la aprobación de la ley de racionalización tendemos que a mayor competencia mayor autonomía el artículo diecisiete establece hasta treinta y siete materias frente a las quince en la legislación básica sobre que la legislación sectorial tendrá que determinar

de ejecución y además estas no tienen carácter cerrado importante importante señor pastor este sistema competencial

fue analizado minuciosamente por eudel y acordado con ellos asociación

respecto a la financiación evidentemente sin una financiación suficiente y adecuada a las competencias atribuidas no se pueden hablar propiamente autonomía local el punto de partida es claro la financiación municipal de euskadi

respecto a la participación de los municipios en el consejo vasco de finanzas públicas la ley supone un avance enormemente significativo respecto de la situación actual pasando de ser meros oyentes a ser miembros de pleno derecho en las materias que les afecte e importante y novedoso también

por todas las instituciones que han participado en el proceso de elaboración del proyecto eudel incluida

con los dos últimos proyectos de la ley municipal y creo que hay que poner en valor este acuerdo alcanzado

maximalistas de cada nivel institucional también se pactó con eudel que todo lo que se está haciendo hasta la aprobación de esta ley se considera financiado si bien la disposición transitoria

para ver su adecuación y por otro lado que las nuevas competencias que se atribuya

también se afrontan en esta ley reivindicaciones históricas de los municipios como son la cartera de servicios

y las ayudas de emergencia social beste aldetik euskerari dagokionez

izanda en materia de transparencia y participación

con eudel y el criterio ha sido el de no por establecer más obligaciones en esta materia estás van a ser cumplidas por los municipios estamos ante doscientos cincuenta y uno realidades distintas

que fijar unilateralmente objetivos muy ambiciosos que luego puedan ser sistemáticamente incumplidos

señor maneiro a usted me referiré brevemente en correspondencia a su escaso interés demostrado durante la tramitación parlamentaria de esta importante ley

pero no solo eso sino que su modelo uniformador que pretende la eliminación

de ningún otro grupo parlamentario ni tiene el respaldo social de la ciudadanía ningún alcalde ningún concejal ningún juntero ello puede ser la causa y a la vez el efecto de su desconocimiento de la realidad

y de las verdaderas necesidades de nuestro mundo local respecto al grupo popular la señora garrido insiste en el retraso en la remisión del proyecto incumpliendo el calendario legislativo

en primer lugar que siendo el gobierno vasco conocedor de que en madrid se estaba elaborando por el partido popular la ley de racionalización era cuando menos prudente

del dos mil trece cuando se aprobó esta ley y asimismo por otro lado también había un mandato parlamentario al gobierno vasco de búsqueda del consenso institucional en esta importante materia

de la noche a la mañana hay temas que trataré de dejar para el segundo turno por el tiempo habla de clarificación competencial

la ley esta ley sigue el modelo de la ley de racionalización aprobada por su partido y que a la vez daba por bueno el modelo de la ley básica de régimen local socialista del ochenta y cinco y de sus enmiendas al título tres y más concretamente de las interpuestas al artículo diecisiete que son ocho no plantean cambios sustanciales o de calado

se refieren a añadir referencias legales innecesarias y creo que inoportunas de cara al proceso o a la evolución de la ley habla de que no se han incidido debidamente

se recoge íntegramente su enmienda trescientos seis sobre lo que se entiende por duplicidad a los efectos de la ley

es un elemento vital para garantizar la autonomía municipal

respecto al euskera a la preocupación manifestada por el euskera decirle que estamos hablando de servicios públicos da igual la forma de prestación del servicio y se aplicará lógicamente en función de la naturaleza y objeto del contrato no es lo mismo un contrato de obras para hacer una carretera

respecto a transparencia y participación ciudadana muy interesante hablaremos en el segundo turno porque no tengo tiempo

la reunión de la comisión en la que tanto eh bildu como nosotros le instamos a que se leyese bien la disposición transitoria y sigue insistiendo

el articulado dice que es optativo es un hecho evidente que los ayuntamientos algunos ponen más dinero

pero no se obliga sino que se va a financiar va a haber un régimen transitorio de ayudas adicionales por un periodo máximo de tres años respecto al grupo socialista respecto al sistema competencial que se recoge en la ley como ya hemos dicho fue acordado con eudel y sigue el modelo de la ley de bases de régimen local aprobado por el partido socialista en mil novecientos ochenta y cinco señor pastor

de partido esencialmente municipalista que bildu lo ha puesto un poco cree sinceramente que la sociedad vasca va a entender que el partido socialista defiende el principio de autonomía local más y mejor que la asociación de municipios vascos en lo referente

intentaré contestarle en el segundo turno y en materia de financiación afirma que los ayuntamientos

el partido socialista ha gobernado muchos años en españa con mayoría absoluta y

paritario en españa entre la administración del estado y las comunidades autónomas para decidir su financiación

tampoco conozco igual sí lo hay me lo dice tampoco hay un órgano paritario entre

dónde está esa igualdad de condiciones que reclaman en euskadi se trata de defender la autonomía local respetando al resto de instituciones respetando el equilibrio institucional

presentando una proposición de ley de modificación de la ley de territorios históricos habría que modificar el marco jurídico pero no solo la ley de territorios históricos como mínimo el estatutario y quizás

interés en esta ley por parte de un servidor usted me lo dice a mí escaso interés por qué no me tiene que explicar por qué considera usted que yo tengo escaso

nosotros analizamos profundamente el contenido de aquel proyecto de ley y tuvimos la valentía suficiente como para presentar una enmienda de totalidad que fue debatida en este parlamento en julio y en la correspondiente diputación permanente y en esa enmienda de totalidad explicábamos perfectamente por qué considerábamos que ese proyecto de ley no servía a los intereses vascos

luego ya no tenía ningún sentido participar en una ponencia que iba

ha quedado perfectamente claro con la posición de los diferentes grupos lo que se propone lo que se proponía y lo que se pretende es encajar esta

reiterada por parte de distintos grupos en la arquitectura institucional vasca el traje foral que padecemos eso era lo que se proponía y nosotros con aquellas enmienda de totalidad lo que dijimos no estamos de acuerdo con este entramado institucional

uno entre setenta y cinco no me importa defiendo mis argumentos igualmente estoy convencido de ellos y creo que

necesita una profunda reforma de su entramado institucional que debe incluir por cierto la correspondiente reforma de la constitución española

la supresión de las diputaciones forales la supresión de las juntas generales de los territorios históricos y la fusión de los municipios quiere usted que se lo repita nuevamente todo eso es lo que llevamos defendiendo siete años por cierto algún partido político ya ha empezado a proponer cambiar el nombre de las diputaciones provinciales

quizás en breve se proponga también la supresión de las diputaciones provinciales

suprimir las diputaciones forales porque no tienen ningún sentido y observe

que una comunidad de apenas dos millónes de habitantes tenga cuatro gobiernos cuatro parlamentos tres políticas fiscales diferentes y para coordinar todo eso un buen número de órganos de coordinación esto no tiene ningún sentido yo entiendo que estas ideas a usted

esto de fusionar municipios es una idea que usted en fin se le queda lejos no la comparte no la entiende

en todos los países de nuestro entorno en los principales países europeos se ha llevado a cabo este proceso yo entiendo que usted eso no lo comprenda que no lo entienda pero es la mejor solución para poner a disposición de los ciudadanos los recursos públicos se trata de tener las instituciones necesarias y ponerlas a disposición de los ciudadanos más allá de derechos históricos y en fin ideas

semejantes entiendo que mi discurso es revolucionario

ideas progresistas buenas para la sociedad se trata de llevar a cabo todas esas reformas y esta ley municipal es un parche más

que padecemos que nosotros no vamos a defender nunca

lo más sensato es llevar a cabo todas esas reformas que la foralidad no nos condicione la vida que seamos capaces de superarla

a disposición de los ciudadanos las instituciones suficientes y necesarias para que esos ciudadanos puedan recibir los mejores servicios públicos posibles esta ley municipal por lo tanto no es nada más que un instrumento que pueda ser encajado dentro de ese edificio foral enhorabuena tienen ustedes una ley consolidan de esa forma

no cuenten con mi voto y ni al parecer con tampoco algunos otros votos de otros grupos políticos se consolidan por lo tanto

con esta ley las todo poderosas diputaciones forales se consolida la foralidad no se lleva a cabo una clarificación suficiente de las competencias municipales no se garantiza la autonomía municipal plena y no se garantiza la igualdad de los ciudadanos vascos independientemente del municipio

estas son las ideas las defendí en la enmienda de totalidad las he defendido durante siete años lo que no voy a hacer es

en una ponencia que no quiere abordar todas esas reformas es decir que no voy a perder el tiempo con usted para hablar

o veintisiete mis ideas son buenas son progresistas ténganlas en cuenta y en fin hable con respeto en todo caso

estas ideas tan buenas de upyd usted no las entiende

que son buenas mire también a europa y lo que hacen los principales países europeos viaje el nacionalismo y el foralismo se curan

lezioak ez ditugu onartuko desde luego que sale esta ley parece que va a salir con cuarenta y ocho votos de setenta y cinco

por los nacionalistas para los nacionalistas no creo que eso sea motivo de satisfacción para un gobierno para un lehendakari cuyo socio preferente era el partido socialista y pensaba sacar esta ley con el partido socialista

muy distintas para poder acordar cuestiones concretas en relación a esta ley y después de las elecciones generales y del batacazo de eh bildu en las elecciones generales pues se encuentra con la urgencia eh bildu de necesitar necesitando hacer una política más

y por lo tanto acuerda usted se incorpora a la ponencia tarde porque se incorpora cuando sale su compañera la señora

diputada en el congreso de los diputados pero los que hemos estados en esa ponencia de catorce sesiones yo tengo que decir que he faltado una y reconozco que he faltado a una

con otras responsabilidades también en este parlamento la posición no era de acercamiento entre eh bildu y el partido nacionalista vasco para nada es más el partido nacionalista vasco en esas reuniones

cortejando a los dos partidos con los que tenía más opciones de poder sacar esta ley adelante que eran el partido socialista y eh bildu

resultado de las elecciones generales cuando viene el acuerdo en eudel y cuando viene la necesidad de pactar

de eudel pero la posición de eh bildu hasta ese momento no fue de acercamiento en los postulados de esta ley usted no estaba y además usted sabe que precisamente se llegaban con las transacciones ya

transados y que por lo tanto ya estaba hecho y cocinado el tema por lo tanto ha habido una

se nota claramente en muchos de las previsiones de esta

que no la sacaba porque la enmienda de la totalidad la discutimos en julio se habilitó el mes para discutir la enmienda de totalidad nosotros tuvimos una posición constructiva no votamos la enmienda a la totalidad no la

veintitrés proyectos de ley en todo caso se referirá a los aprobados en el consejo de gobierno

de veintinueve proyectos de ley que usted dijo que se iban a aprobar en esta legislatura en su calendario legislativo al entrar en este parlamento teníamos cinco aprobados

el estatuto de las mujeres agricultoras el de quinta modificación de la ley de parlamento vasco y el de espectáculos públicos y actividades recreativas ahora tenemos seis

pero no veintitrés señor lehendakari veintitres habrá aprobado usted si son veintitrés que habrá que cotejarlos pero leyes aprobadas de los proyectos de ley tenía previstos en el calendario legislativo seis hasta ahora hasta este mismo momento por lo tanto el balance de gestión deja mucho que desear señor lehendakari

nos intente vender otra cosa y por mucho que usted intente hacer demasiada propaganda últimamente no sé si en vistas

electoral que todavía por cierto queda mucho por hacer y sobre todo con vender intentar tapar la inacción en materia de gestión y de producción legislativa que se ha visto claramente con el balance de las leyes aprobadas de los compromisos que usted adquirió por lo tanto no nos diga compromisos

que usted prometió solo hasta ahora seis leyes aprobadas

hacía referencia el señor zorrilla al consenso institucional bueno consenso

efectivamente nosotros hemos entrado en algún acuerdo en alguna transacción

le decíamos la posición claro es que la posición final estaba condicionada también

que finalmente fue con eh bildu en el tema de las ayudas de emergencia social

porque cuando incorporan este régimen transitorio ustedes hablan de la revisión del sistema vasco

artículo de una ley o sea una chapuza monumental hablan de un diagnóstico específico

que luego se llevará para debate y que tendrá que estar un texto

que luego también se pondrá a disposición de otra comisión es decir una absoluta chapuza y por mucho que usted me quiera decir

con la previsión que finalmente contemplan en esta disposición transitoria acordada entre ustedes dos la responsabilidad del gobierno vasco en el pago de las ayudas sociales

mejor dicho no en la última modificación cuando se aprobó y específicamente en el artículo noventa y uno

obligado a consignar las cantidades necesarias cuando los ayuntamientos no cubrieran sus necesidades de demandas en las ayudas de emergencia social por lo tanto ustedes con esta chapuza que han hecho aquí de tanto estudio de tanto informe y de forma transitoria

ustedes claramente quieren diluir las responsabilidades que tienen como gobierno en sufragar estas ayudas en definitiva falta de ambición falta de liderazgo una oportunidad perdida podríamos haber ido mucho más allá en muchísimas cuestiones y por supuesto

estos meses en la tramitación en el parlamento vasco hábleme del retraso de esta ley en llegar al parlamento vasco

con un texto aprobado después de que ustedes han estado menos cuatro años todos los años
en el gobierno vasco eskerrik asko garrido anderea

gracias bueno yo lo que he podido constatar es que ni los señores de bildu ni los señores del pnv

respecto al papel de dependencia que los ayuntamientos siguen teniendo respecto a lo foral ni uno de ustedes

yo pensaba creo que pensábamos todos que aquí estábamos hablando de una ley para reforzar la autonomía municipal y para colocar a los ayuntamientos en el lugar institucional que le corresponde es decir en pie de igualdad con las otras dos administraciones la

y los territorios históricos y resulta que ahora tenemos un nivel es verdad

que son los ayuntamientos eso es lo que consagra esta ley por mucho que el señor maeztu salga aquí muy nervioso intentando

y ustedes se lo han vendido muy barato y entonces han preferido hacer el acuerdo con ustedes porque les han comprado la totalidad de la cesta de la compra menos dos pimientos pochos eso ha sido su acuerdo

ustedes el mismo día que firmaron el acuerdo salieron diciendo que habían conseguido dos logros históricos

con voz y voto de los ayuntamientos en el consejo vasco de finanzas pero si eso estaba en el proyecto original presentado por el gobierno segunda cosa que era un elemento de relumbrón

tengan capacidad de consultas vinculantes coño como toda la vida yo he sido alcalde y he convocado consultas que son vinculantes si así lo decide el ayuntamiento en el ámbito de su competencia

por lo tanto si esos son los logros que han conseguido ustedes pues en fin que venga dios y que lo vea yo no las veo por ningún sitio

después de haber aceptado que los ayuntamientos no tienen capacidad de decisión real sobre sus finanzas porque me reconocerá que ley dice que tienen carácter de recomendación en política fiscal así

por lo tanto si es recomendación no es vinculante y si no es vinculante no tiene usted capacidad de decisión

porque vamos a decidir sobre la ley vasca de aportaciones mentira léase el texto

la capacidad de participar en las discusiones para la elaboración de la nueva ley pero discutir no es decidir es solo discutir

o le viene mal el trabajo que se ha hecho y luego con las aes léase usted por favor

léaselo porque ya en la comisión lo dijo usted mal no es cierto que se diga que a los ayuntamientos pequeños el gobierno vasco les paga dos tercios y ellos un tercio no

y el gobierno como máximo otros treinta por ciento respecto a la cuantía inicial

el gobierno vasco paga lo mismo pero los ayuntamientos ponen un cincuenta por ciento eso es lo que viene en el texto de la enmienda que ustedes han pactado y que aparece escrita

lo que usted ha dicho es una interpretación muy generosa pero que no responde a la realidad de los hechos

porque en esta comunidad afortunadamente tenemos más recursos disponibles y por lo tanto tenemos más capacidad de reparto a los ayuntamientos y no me ponga el ejemplo andaluz no haga otra trampa eso es otro campo de juego allí no hay concierto económico

y las relaciones en la ley andaluza ayuntamientos gobierno son de tú a tú ayuntamientos gobierno fíjese que fácil y que sencillo sin elementos intermedios

porque tienen menos recursos económicos disponibles que los que tiene afortunadamente nuestra comunidad autónoma por lo tanto realidades que no son homogéneas no pueden compararse

pero en cualquier caso yo pongo en valor como lo hemos puesto que haya una ley

pero es mala podía haber sido mucho mejor se han perdido muchas oportunidades en el camino si yo entiendo la postura del pnv quieren salvaguardar a toda costa a las diputaciones forales pero si han sido las que han tumbado todos los proyectos municipales que en el mundo han sido salvo el último porque a usted se le ha olvidado decir que recurrieron a la comisión arbitral pero la comisión arbitral dio la razón

respecto que aquel proyecto no invadía las competencias municipales ustedes han recogido las alegaciones previas de las diputaciones

porque de municipal tiene poco eskerrik asko pastor jauna

ha llegado el momento también de seguir desmintiendo las mentiras que vienen repitiendo ustedes

en este tema desde que se llevó a comisión y ahora aquí en el pleno el tema de las ayudas de emergencia social yo creo que está el texto y se va a leer y está muy claro

de la asignación inicial por encima de la asignación inicial un tercio lo asumen ellos

en el cien por ciento y eso viene tal y como lo estoy diciendo en la propia ley

cincuenta cincuenta hoy en día tienen que asumir el cien por ciento pero hablaba usted de acuerdo barato sabes lo que supone esa cláusula en millónes a lo que en el dos mil quince han tenido que pagar los ayuntamientos tres coma ocho millónes de euros más que va a tener que poner el gobierno vasco en esos presupuestos

de un millón de euros viene aquí con toda su jeta el que pactó un millón de euros para ayudas de emergencia social viene aquí

en la negociación de la ley municipal que nos hemos bajado los pantalones

es impresionante no hemos metido nueve rotondas

en esos acuerdos caros que hacen ustedes tres coma ocho millónes de euros en las ayudas de emergencia social supone esa cláusula hagan cuentas y mírenlo

que usted nos hable de una ley que va a salir con un apoyo de cuarenta y ocho parlamentarios

de gobiernos de alcaldías le voy a recordar una ley que se aprobó la pasada legislatura aquí

con treinta y ocho salió los que tenía el partido socialista y el partido popular para qué

y bajar la cantidad de preceptores de las ayudas sociales vienen ustedes aquí también quienes firmaron ese acuerdo a decir que han conseguido tres coma ocho millónes en la negociación de la ley municipal

que estamos haciendo cesiones al gobierno en temas de ayudas sociales

y para acabar los ayuntamientos desde el inicio de este proyecto de ley es cierto tenían voz y voto en el consejo vasco de finanzas lo que se ha definido es en qué aspectos van a votar

en los coeficientes horizontales no lo he querido decir así porque entiendo que la gente no entiende que son los coeficientes horizontales pero es una vez hecho el coeficiente vertical el reparto gobierno vasco y diputaciones van a tener voz y voto a la hora de decidir cuánto va a cada territorio histórico no luego en los territorios históricos

los decidan mediantes sus representantes en el consejo vasco de finanzas pero es que en la caja general van a decidir con voz y con voto

y que participen en igualdad con el gobierno vasco y las diputaciones forales en el reparto de los recursos generales de este país eta bukatzeko

eskerrik asko bueno desde nuestro punto de vista

de la misma y que configura el municipio como un autentico gobierno local

amplio material de actuación hasta treinta y siete materias y que además no es cerrado

que promuevan y aprueben las distintas instituciones locales de todas sí luego entraré con eso señor

y regula su presencia en el consejo vasco de finanzas como miembro de pleno derecho por lo tanto estas cuatro cosas

ni por separado se encuentra en ninguna legislación local que esté en vigor en todo el estado

señor pastor tranquilo ya sé que no puede contestar será una pregunta retórica

las que cumplan alguna de estas cuatro ninguna señor pastor ninguna

gracias a nuestros derechos históricos y nuestra singularidad foral y a las gestiones realizadas por el pnv en madrid para excepcionar la aplicación

anteriormente respecto a los comentarios de la señora garrido que yo sí he estado en todas las

hable de lo que sepa respecto a la designación de los miembros

y en el consejo vasco de finanzas ustedes plantean una fórmula y puede haber muchas fórmulas la suya

no sé si en base a alguna tutela foral también podría ser democrático que se los designase este parlamento o la fórmula planteada por el partido socialista suponemos que en aras a la democracia y a la pluralidad

partido político de los tres que hubieran recibido más votos en las elecciones locales nosotros y bildu también compartimos

que es lo que trata esa ley es que sean los propios ayuntamientos los que a través de su asociación la asociación

elijan a sus representantes respecto a las entidades locales hablaba de las cuadrillas y concejos yo creo que falta la verdad como suele decir usted yo creo que tanto euzko abertzaleak como bildu

y con el título el título demuestra que se han tenido en cuenta en cuanto a transparencia y participación ciudadana muy interesante esta materia es cierto que le han dado mucha relevancia a la transparencia de hecho noventa de sus

y es curioso el proceder del partido popular en esta materia ya que fijan por legislación básica los mínimos de transparencia y luego plantean incrementar esos mínimos cuando no les toca a ellos y sin conocer la opinión de los afectados un ejemplo claro son las obligaciones de transparencia

establece hasta el apartado k mientras que el artículo seis de su ley de transparencia estatal regula dos apartados sobra las obligaciones de esta materia y también cuando menos es curioso que el grupo popular

y sobre todo cuando las obligaciones son para otros no hay más que ver cómo está actuando este mismo partido el partido popular en madrid donde el gobierno en funciones del señor rajoy en un claro ejercicio de opacidad se niega al control parlamentario al control de representantes de la ciudadanía y a dar cuenta de su gestión así que menos predicar transparencia para otros y aplíquense el cuento señores y señoras del partido popular

es una cosa que repite constantemente creo que ya ha quedado claro que el gobierno ha cumplido remitiendo

proyectos el ejemplo es esta ley remitida el día doce de noviembre del dos mil catorce

este grupo presentó doce propuestas de transacción al grupo popular

no se hizo hasta la última reunión de la ponencia incluso alguna después no sé

del gobierno o del parlamento y en este caso habrá que analizar cuáles son

de quererles llevar a machaca martillo literalmente y en algunas leyes ustedes han pedido ampliación de plazo para luego no presentar las enmiendas correspondientes

lo que traía el texto legal en la disposición transitoria séptima que simplemente con una lectura una nueva lectura probablemente y con las explicaciones que ha dado el señor maeztu pueda ser aclarado y me queda solo

la ley se puede aprobar en estos términos precisamente gracias a nuestra singularidad foral como ya he mencionado

autónoma como no lo hacía tampoco el proyecto socialista es decir que es necesario respetar el marco jurídico institucional vasco dice estar en desacuerdo con que al consejo vasco de políticas públicas locales y a la comisión de gobierno locales se les hurte la posibilidad de participar e intervenir ante iniciativas de territorios históricos que puedan afectar a las competencias municipales respecto al consejo vasco de políticas públicas he de decirle que por más que he mirado el título quinto artículos treinta y nueve y siguientes de su proyecto el proyecto aprobado la pasada legislatura

era un órgano paritario entre gobierno y municipios únicamente y ahora a diferencia de aquel los territorios históricos sí que participan en dicho consejo no sabemos si ello se debe a algún pase foral o a la necesidad de ganarse el apoyo de su socio de gobierno y respecto a la comisión de gobierno locales

ubicado en el título primero de la ley interpretativo de las disposiciones del título séptimo que garantiza el derecho a que en cada nivel institucional se forme esta comisión de gobierno locales y a mayor abundamiento fue el representante socialista de eudel según dicen las actas del grupo de trabajo vicepresidente para más señas el que mantuvo una posición contraria a la que ahora defiende el grupo socialista defendiendo básicamente que no veía la razón para que un municipio guipuzcoano o alavés opinara sobre una norma foral

al que se unió la diputación foral guipuzcoana por tanto y finalizando nos llama la atención poderosamente que un mismo texto legal un mismo proyecto de ley le sirva a unos al grupo socialista para decir literalmente

para decir que la nueva ley va a rebajar las competencias de instituciones forales

y escuchados algunos argumentos parece que se ha conseguido el difícil equilibrio entre los tres ámbitos institucionales de la arquitectura institucional vasca y todo ello dentro del marco jurídico vigente

con una situación de bloqueo y división aquí en euskadi el acuerdo entre diferentes es posible se dialoga se negocia para construir para consolidar a nuestras instituciones en este caso a las instituciones a las entidades locales

muchas gracias presidenta un placer señor consejero isiltasuna eskatzen dizuet mesedez

vaya por delante que nos hubiera gustado que los promotores de esta iniciativa legislativa popular hubieran tenido ocasión de defenderla en el pleno en el inicio

en la ponencia que hubieran podido tener presencia en la comisión donde se debatieron las enmiendas de los diferentes grupos

en el pleno de hoy para que pudieran exponer sus argumentos y pudieran defender con su voz no con su voto las medidas planteadas en esta iniciativa

la proposición de ley planteada en su momento registrada por upyd y que está en curso en este parlamento pueda ser aprobada cuanto antes para que todo esto sea posible

paso a recordar las dos razones por las cuales votamos a favor de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular cuyo recorrido finaliza hoy primera

lo cual no significa que tuvieran razón en todo lo que proponían ni en el modo de proponerlo pero sí era un número lo suficientemente elevado de firmas como para al menos

y luego a través de enmiendas parciales de los diferentes grupos tratar de mejorarla y dos porque la ilp tocaba un asunto sensible que incidía en las condiciones laborales y sociales en las subcontratas de las administraciones públicas el problema es que el objetivo de los promotores era más mediático que político o legislativo

parlamento no tiene competencias legislativas ni en contratación pública ni en legislación laboral el problema es que el texto propuesto inicialmente era inconstitucional el problema es que la ilp incluía propuestas ilegales propuestas inconstitucionales

vulneraban la legislación básica más allá del título lo que pretendía la ilp era que esta cámara pudiera legislar en materia de convenios colectivos

para todo tipo de contratación es decir la ilp nos proponía imposibles envuelto en un discurso social y que en un primer momento pudiera parecer

imposibles por ello nosotros presentamos ocho enmiendas que tenían como objetivo frenar estos excesos corregirlos y tratar también de acordar un texto alternativo con los diferentes grupos parlamentarios finalmente el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos un acuerdo razonable en palabras del señor itxaso una fórmula que posibilite que mediante un instrumento normativo en este caso con fuerza de ley el sector público vasco pueda incorporar cláusulas sociales debo decir que el texto acordado entre el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialista nos parece razonable más allá de las enmiendas planteadas por upyd que seguramente sean rechazadas por el resto de grupos más allá de que tuvieron una buena consideración en los debates previos

entre el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialista nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

buenos días efectivamente es el trámite final para la aprobación de una iniciativa legislativa popular

eso nos llevaría necesariamente a plantear dos cuestiones una

y una segunda cuestión si la iniciativa legislativa popular trataba realmente de este hecho y de esto es de lo que queremos hablar hoy los socialistas en esta cámara tratando nada más y nada menos que de una iniciativa legislativa popular y comenzaré

cómo se llamaría al hecho de recoger firmas para una iniciativa legislativa sobre la que no tenemos competencia legislativa dejo formulada la pregunta para que cada cual

porque el principal argumento de autoridad de los postulantes es efectivamente que hay ciento diez

y que eso hace que la propuesta no pueda ser rechazada por mor de la multitud que la

y antes de entrar en el contenido de lo que es la ilp conviene hablar siquiera someramente de lo que son las cláusulas sociales en la contratación

de mano de las directivas europeas que vienen a decir en definitiva que la inclusión de condiciones sociales laborales o medioambientales en la contratación pública pueden constituir un factor o herramienta al servicio de los poderes públicos

de sus fines o políticas públicas es una forma de intervención de los poderes públicos en la vida económica social y política pudiéndose orientar comportamientos destinados a los agentes económicos que se tratan de favorecer de manera que al final en todo este acervo jurídico europeo

la idea de la oferta más ventajosa de los licitadores por la idea de la mejor relación calidad precio

de qué son las cláusulas sociales en la contratación pública son necesarias para a continuación

analizar si lo que propone la ilp es verdaderamente una cuestión de esta naturaleza

el portavoz el señor maneiro de upyd no tenemos competencia legislativa en materia de contratos

y en cuestiones laborales ni siquiera la tenemos de desarrollo legislativo solamente de mera ejecución por lo tanto plantear que una ley pueda recoger este tipo de cosas nos parece simplemente que no tenía posibilidad de recorrido alguno porque

hablamos de cláusulas sociales pero la iniciativa legislativa popular solo hacía mención a dos cuestiones nucleares la cuestión de los convenios y la cuestión de la subrogación

para empezar está recogida en el estatuto de los trabajadores y sobre cuál es la preferencia de aplicación

nosotros no podemos como legisladores invadir un ámbito de la negociación colectiva y esto pasa lo mismo con la subrogación que como se ha dicho por el portavoz anterior se planteaba que fuera indiscriminadamente para todo tipo de contratos servicios suministros obras cuando resulta que la subrogación

sucesiones de empresa en el artículo cuarenta y cuatro solamente sucesiones de empresa

tribunal constitucional que dice claramente que

sucesión de empresas quien si habla de la subrogación

del sector público que habla en el caso de que se produzca la subrogación

el origen legal es decir basado en el estatuto de los trabajadores si hay una sucesión de empresas o un origen convencional es decir si hay un convenio colectivo que así lo recoja y de nuevo entramos en el ámbito de lo que es la invasión de aspectos que forman parte de la negociación colectiva hay un hecho muy reciente

precisamente al sindicato ela en el asunto de los trabajadores de e i te be y qué dice el tribunal constitucional pues justamente que la ley de presupuestos en las que se les

tenemos un ejemplo claro de que el legislador aquí allá y acullá no puede entrar en aspectos que están reservados exclusivamente para la negociación colectiva pero claro

hablamos de convenios colectivos de naturaleza estatutaria que son aquellos que firman precisamente las centrales sindicales más representativas pero es que resulta que aquí justamente en euskadi tenemos la tasa de cobertura por convenios menor de toda españa de todo el estado es decir

nosotros hemos llegado a un acuerdo como se ha dicho con el partido nacionalista vasco pese a que tenemos muchas discrepancias que a lo largo de los debates que se han suscitado en esta materia se han manifestado le reprochábamos al gobierno en la toma de consideración

de la misma manera hay un acuerdo de dos mil trece en el que se le instaba al gobierno a redactar un pliego de cláusulas generales en las que se incluyeran cuestiones referidas a los convenios

que en comisión de hacienda tuvo lugar y desde luego no tuvimos la más mínima oportunidad de ser asesorados en nada porque a las preguntas nucleares sobre si era posible legislar en esta materia la respuesta fue

sin embargo hemos llegado a este acuerdo con el partido nacionalista vasco porque nos ha parecido a los socialistas que

después de todo este recorrido era necesario que al menos saliera un texto que fuera viable dentro de las limitaciones y ese es el texto que como se ha dicho hemos convenido que seguramente a ojos de los patrocinadores les parecerá

porque nosotros podíamos haber hecho otros acuerdos seguramente muy pro soviéticos muy bolcheviques pero tampoco habrían salido por la aritmética parlamentaria y por otra parte nosotros

decir tengo derecho a intervenir en la política por supuesto todo el mundo

y esto lo digo porque claro para empezar haría falta también que la propia central asumiera sus propias responsabilidades sindicales porque como he dicho ni siquiera la negociación colectiva que tanto se invoca

sindical y con esos planteamientos que por cierto priorizaban

pero lo décimos en fin porque siempre hay que conceder el beneficio de la duda

realmente dudas no tenemos ninguna entre otras cosas por qué porque aquí hay una ley

y dice claramente en el artículo dos quedan excluidas de la iniciativa legislativa popular cuáles aquellas materias sobre las que la comunidad autónoma

vaya hombre si estaba tan claro por qué hemos hecho todo este recorrido nosotros lo hemos hecho porque el debate nos parece importante porque la cuestión es verdaderamente trascendente que la contratación pública sirva en el futuro para orientar determinadas políticas públicas pero si alguien queda

debe de tener la garantía y la seguridad de que no va a ser por insuficiencia porque

que acaba el plazo para la trasposición de las directivas europeas en materia de contratación

efecto directo vertical y se podrán plantear y se podrán los poderes adjudicadores llevar adelante los procesos de adjudicación en base a lo que dicen

de que los estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos públicos los operadores económicos cumplan las obligaciones en materia medioambiental social o laboral y luego en una serie de considerandos habla precisamente de la sujeción a los convenios esta garantía

que en aplicación de las directivas tiene toda la virtualidad posible que la pretensión de los postulantes quizás

pero viene de la mano como digo de esa normativa europea y lamentar en todo caso que en este trámite hayamos podido transitar con unas dudas que no tenían porqué porque nosotros no hubiéramos hechos ascos a que el debate tuviera lugar

lo que nos parece inaceptable es que ni el gobierno haya hecho una referencia que suele ser una cláusula habitual y de estilo en toda toma en consideración sobre si tenemos título habilitante o no no lo hizo la junta asesora de contratación también

y resulta que tenemos una ley que habla de la iniciativa legislativa popular que excluye claramente todas aquellas cuestiones sobre las que no tenemos competencia y en este caso hablamos de contratación pública y de asuntos laborales de derecho laboral por lo tanto

que el acuerdo alcanzado es no sé si el mejor posible pero es el que era factible

que es una de las razones por las que nos hemos avenido también a ese acuerdo

de la licitación pública disparan los despidos en la construcción

un centenar de empleos en los últimos meses cerca de doscientos trabajadores están en ere o a punto de entrar en ello hori da

ez dela krisia sortu duena ezta lan erreformaren arduraduna ere nuestro grupo como lo ha hecho nuestro partido en las instituciones que gobierna siempre ha intentado

todo lo posible la producción de ese tipo de situaciones socialmente inaceptables pero con los pies en el suelo buscando la adecuación entre los fines perseguidos y los medios a su alcance como lo hacemos ahora con esta iniciativa en el marco de nuestras competencias en materia de contratación pública

nos ofrecían alguna pista sobre la verdadera finalidad de lo que proponen

para comprender que se centra exclusivamente en determinados aspectos laborales de la contratación pública en esta línea

que las condiciones recogidas en el texto del convenio colectivo territorial conformarán las condiciones mínimas

las actividades objeto del contrato con independencia de que el mencionado convenio hubiera perdido vigencia por

del estatuto de los trabajadores se pretendía así de modo manifiesto actuar sobre una materia de naturaleza claramente laboral como son las relaciones entre empresario y trabajador y lo hacía a nuestro entender para alterar las determinaciones

pero pretende alterarla desde el ámbito de la contratación pública y la contratación pública señorías tiene otra finalidad tiene por objeto regular la contratación del sector público adaptándola a las directivas comunitarias a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad y al acceso a las licitaciones

y no discriminación a la igualdad de trato entre los candidatos asegurando una eficiente utilización de los recursos públicos mediante la salvaguarda de la ley de la competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa además

enumera una serie de negocios y relaciones jurídicas excluidas de su ámbito de aplicación

por sus normas especiales mientras que se halla los contratos regulados en la legislación laboral

en tal sentido en la propia ley de contratos se contempla que los aspectos sociales pueden ser tenidos en cuenta mediante las denominadas cláusulas sociales de la contratación pública pero qué son las cláusulas sociales de la contratación pública señorías

son estipulaciones que obligan a los adjudicatarios de un contrato

además del objeto propio del contrato pueden referirse a consideraciones tales como promover el empleo de personas

combatir el paro favorecer la información en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan

para el empleo definido en el artículo ciento cuarenta y cinco del tratado de la unión europea

mediante la exigencia del cumplimiento de las convenciones fundamentalmente de la oit

en los que se incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato

pero que tienen como límite el que no sean contrarios al interés público al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración

siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico es decir que los pliegos deben someterse a las leyes en relación con el respeto de los pliegos de condiciones a las leyes unas notas sobre la reforma laboral

ha modificado sustancialmente la ley de salud de los trabajadores

prioridad aplicativa al convenio de empresa o al convenio del grupo de empresas

entre otras en las siguientes materias salario base y complementos salariales

horario y distribución del tiempo de trabajo medidas para la conciliación de la vida laboral familiar y personal es decir

ha perdido su prioridad aplicativa por prevalencia del convenio de empresa por tanto no se puede exigir

el cumplimiento de las materias citadas anteriormente e incluidas en un concreto convenio colectivo territorial distinto a aquel que rige en la empresa se pretendía imponer a todas las empresas adjudicatarias el sometimiento a unas condiciones laborales

y nosotros entendemos que las condiciones de trabajo en una empresa la fijan los trabajadores y el empresario no un tercero ajeno a la misma como es la administración que adjudica una obra o un servicio a la citada empresa frente a esa propuesta

nuestras enmiendas y las del grupo socialista que tiene las siguientes características en primer lugar

más allá de los aspectos laborales que contenía la ilp inicial

tanto en lo referido a los ámbitos subjetivo como al objetivo de aplicación de la norma ya que la relación inicial inducia a errores de igual modo

los supuestos de contratación subcontratación y subrogación y se establece un régimen específico para cada uno de ellos

deba declararse desde el momento de la presentación de la oferta que sea objeto de publicidad general estableciéndose mecanismos para controlar que se corresponde con el convenio que de acuerdo con la legislación laboral debe aplicarse

la obligación de que una vez adjudicado el contrato la empresa adjudicataria no proceda de manera unilateral a realizar modificaciones que impliquen una minoración de las condiciones laborales aplicables a los trabajadores adscritos a la ejecución de ese contrato respecto a la subrogación se establece la obligación de que el nuevo adjudicatario

que realice las actividades que van a tener continuidad con motivo del futuro contrato

se establece un mecanismo por el que los licitadores pueden obtener información

que son de aplicación al contrato de que se trate y finalmente se indican las reacciones en caso de incumplimiento que van desde la imposición de sanciones económicas hasta la resolución del propio contrato cuando a estas cláusulas

arautzen duena y respecto de las enmiendas mantenidas para este pleno por los grupos bildu y upyd decir que

fueron expuestas tanto en la ponencia como en la comisión que aprobó el dictamen

participan de los errores y el confusionismo conceptual que provenía

originario y en otros casos pretenden ampliar el campo de actuación a los aspectos ambientales de las cláusulas públicas

y además muchas de ellas las entendemos incorporadas o al menos entendemos que tienen cabida tanto en la habilitación genérica recogida en el artículo cuatro de nuestra propuesta como en la restante normativa sobre cláusulas sociales en la relación pública aplicable hoy en día en nuestra comunidad

al grupo mixto upyd y al grupo popular el apoyo al texto acordado en comisión y asimismo agradecer especialmente al señor itxaso los esfuerzos realizados para alcanzar un acuerdo que hoy sometemos a la consideración de esta cámara besterik ez eskerrik asko

en primer lugar señor maneiro agradecer su voto de confianza también al partido popular desconocía cuál iba a ser su posición

cuestión meramente expeditiva ya lo hicimos saber en ponencia que nos parecían interesantes sus enmiendas lo que pasa es que

con garantías y con seguridad jurídica cosa que no ha pasado en este asunto suelo seguir una máxima que dice que

y tengo que decir que puesto que se ha dicho que el partido socialista se burla de los trabajadores debo contestar a ello

sobre la que no tenemos competencia eso sí me parece una burla porque yo antes he formulado una pregunta retórica

pero yo sí tengo una opinión bastante nítida sobre lo que es eso porque harían falta bastantes menos firmas para una iniciativa legislativa popular pero se han recabado nada menos

pero sobre unos contenidos sobre los que no podemos entrar so pretexto de invalidez absoluta total y demás pero claro eso igual a ustedes señora arrondo les sirve

hacer las cosas con sentido de la responsabilidad y hasta dónde se puede llegar

diferentes acuerdos y con las diferentes posibilidades usted habla de subrogación pero es que no se puede imponer la subrogación no sé cómo debo decirlo la subrogación si surge por ley

de sucesión de empresas no es necesaria que aparezca en ningún pliego de condiciones porque surge ex lege

lo que no puede hacer el legislador es imponer condiciones que forman parte de la negociación colectiva lo que pasa es que claro aquí se pretende que haya esa sustitución porque quienes tienen que ostentar esa interlocución en la negociación colectiva han abdicado de todo ello

para nosotros lo es cuando dice una vez analizada la reforma

en qué quedamos convenios colectivos sectoriales convenios de empresa bueno pues tienen que estar satisfechos porque la preferencia en su aplicabilidad del pacto de empresa está recogida

objeción todos contentos la reforma laboral de rajoy coincide con las pretensiones de esta central y además

de lo que le estoy diciendo prueba cuál es de que esto se ha tratado antes en el parlamento navarro pero el parlamento navarro es que tiene competencia exclusiva en la materia y aun así sabe lo que ha pasado con la iniciativa legislativa popular que allí se presentó todos los artículos han quedado suprimidos todos sin excepción y aunque no he tenido acceso a ellos los informes jurídicos tanto del gobierno de navarra como del parlamento vamos

sobre lo que era el contenido y nosotros pese a toda esta presentación hemos hecho un esfuerzo por tratar el tema porque nos parece importante y así lo hemos declarado

algo al menos que no sabemos si tendrá algún recorrido alguna viabilidad por las dudas que he expresado en la primera intervención pero al menos hay

la obligación de presentar los licitadores el convenio al que van a aplicar pero nosotros no somos quienes tenemos que decir a día de hoy y aquí

preferente aplicación porque eso forma parte de la legislación laboral sobre la que nosotros no tenemos capacidad de decisión más cosas

si ya le digo para el que quede insatisfecho se le abre todo un abanico de posibilidades en marcha de las directivas de contratación que por supuesto constituyen

son directivas muy extensas que exceden desde luego este asunto pero en lo que hace referencia a la inclusión de cláusulas sociales o del sometimiento a los convenios

son los que van a poder establecer porque no olvide usted señora arrondo que esto en todo caso

de carácter dispositivo no es imperativo es decir las mesas de contratación podrán o no incluir cláusulas sociales y verán de qué tipo son si tienen alguna vinculación con el

por lo tanto lo que tengo que decir es que esto ha servido

el fin que se proclama que es ver hasta dónde puede llegar la administración los poderes públicos para que en la contratación pública se puedan corregir todas esas cosas que usted dice y que nosotros compartimos naturalmente que sí pero imposibles o cosas que se sabe que van a encallar desde el principio nosotros a eso no jugamos lo que sí hemos hecho ha sido coger el testigo del debate que nos parece un debate importante y llevarlo al mejor término que hemos creído oportuno nada más

una serie de cuestiones que se ha hecho referencia aquí en el debate sobre la precariedad laboral y la producción de empleo la estabilidad en el empleo no es una materia de contratación pública sino que es materia laboral y este grave problema de la precariedad

que no se resuelven a través de la contratación pública los promotores de la ilp como quien la apoya deben saber y saben que existen reglas de juego a aceptar

revertir la reforma laboral desde la contratación pública no es posible y menos desde este parlamento usted lo sabe sobradamente

que no se pueden conseguir es engañar a la ciudadanía y en este caso a los ciento diez firmantes de la iniciativa

está condenado al fracaso y el mejor camino para cargarse las instituciones seguramente es desprestigiarlas señora arrondo y en ese sentido algunos consciente o inconscientemente están trabajando por ello

lo que no nos parece tan bien es que se limite la posibilidad de contratar personas

trabajadores de empresas de araba no podrían competir con los trabajadores de bizkaia o de gipuzkoa con la propuesta de ustedes

a concursadas en otro territorio por no hablar de los trabajadores que no tienen cobertura en convenio que setenta por ciento de los trabajadores en euskadi o inclusive más los que no tienen empleo

nosotros en respuesta a la pregunta que nos ha hecho que en euskadi pudiéramos elaborar una ley

no es el caso sobre las adjudicaciones el gobierno adjudica la oferta más ventajosa que se apoya en trípode entre precio plazo y calidad de los trabajos y a la administración se le pide que sea eficaz en la gestión de los recursos públicos no sería legal ni políticamente aceptable

pudiéndola obtener por un precio inferior si así lo hiciese sería objeto de crítica social y con razón a nuestro juicio

y opera como tope máximo no hay adjudicaciones señora arrondo al alza normalmente son al tipo o inferiores por tanto siempre si se le exige esa obligación

de este modo se liberan recursos públicos que pueden ser destinados a otros objetivos sociales

isiltasuna mesedez el cálculo de los precios se utiliza como digo en los pliegos de condiciones se tienen en cuenta los precios habituales en el mercado tanto en los costes laborales

sobre los precios de mercado una y otra vez he escuchamos aquí hablar de voluntarismo político

para que el gobierno eluda el cumplimiento de la legalidad pero en política

lo primero es comprender los problemas y el voluntarismo lo que hace es primar la voluntad por encima del entendimiento

me siento más cerca de descartes quien dijo que la voluntad es la causa del error tanto práctico como cognoscitivo por lo tanto los problemas no se pueden resolver si no se conocen y si no somos capaces de delimitarlo y finalmente respecto a la representatividad o la legitimidad los promotores de la ilp ponen énfasis en las ciento diez mil firmas conseguidas y nos acusan de ningunearlas de que son

nuestro más absoluto respeto a los firmantes que han servido precisamente para alumbrar esta iniciativa y que hoy sometemos a la consideración de esta cámara pero del mismo modo

votantes de nuestro partido aquí representados por nuestro grupo parlamentario que

y si sumamos los doscientos once mil del partido socialista la proporción se eleva

no se aprueban en los tenderetes montados en las calles y plazas de nuestros pueblos se aprueban en este parlamento y los promotores tienen la oportunidad si así lo desean de presentarse a las próximas elecciones de este parlamento incorporar en su programa

señora presidenta buenas tardes ya a todos nuestro grupo ha votado favorablemente a esta propuesta

toma en consideración y aunque no nos opusimos a esa toma en consideración y no nos opusimos precisamente por la procedencia que tenía a pesar de que ya en ese momento teníamos muchas dudas sobre la legalidad del contenido de la misma como decía

a pesar de que ha habido otras iniciativas que también han venido a esta cámara respaldadas por un montón de firmas y que sin embargo no han

y desde luego hay que decir que los proponentes de esas firmas

lo que proponían pudo ser objeto de debate fueron bastante más respetuosos de lo que hoy hemos visto aquí y hacíamos

de la voluntad popular de un número de firmas y también porque es verdad que el contenido de la misma el contenido que parecía tener esa iniciativa es un contenido sobre el que

siempre hemos estado a favor de la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública siempre hemos considerado que la contratación pública

de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines de sus políticas públicas y cómo no también

una técnica al servicio de como digo consecución de objetivos sociales ambientales

y de mejora laboral estos criterios han sido admitidos y fomentados no solamente

por nuestra normativa estatal y autonómica que ha previsto la introducción en la contratación pública de consideraciones de tipo social para fomentar

y también para garantizar la introducción de cláusulas relativas a asegurar el cumplimiento de las condiciones laborales en las empresas adjudicatarias de contratos del sector público es importante en este sentido a nivel europeo la directiva dos mil catorce del parlamento europeo sobre contratación pública

considerable avance en esta materia de cláusulas sociales despejando dudas existentes con arreglo a esas

aspecto en el que nuestra normativa ha ido más allá en la ley treinta y uno barra dos mil quince como esta misma semana hemos visto en comisión

ofrecían esa garantía jurídica al exigir el cumplimiento de los convenios colectivos y garantizar

y no solo en la legislación comunitaria también el texto refundido de la ley de contratos públicos aprobado por el real decreto legislativo tres barra dos mil once

este aspecto es más por mucho que se diga de que no se ha traspuesto la directiva gran parte de ese contenido está recogido precisamente en ese texto refundido

en la contratación entre otras cosa porque eso ya era permitido o eso ya se podía

a través de como digo la normativa con la que contamos lo que se pretendía con la misma no era sino dejar sin valor la legislación laboral vigente dejar sin valor la reforma laboral saltarse una normativa aprobada por el congreso de los diputados y hacerlo en una cámara en este parlamento que carece de competencias para ello además esa propuesta ya había contado con un informe desfavorable del gobierno vasco y fue recurrida por la comisión arbitral por la diputación foral de bizkaia por eso como decían nuestro grupo dudas en ese momento nosotros no presentamos enmiendas porque considerábamos como digo que gran parte de lo que está contenido

puede conseguirse sin necesidad de que el texto exista es verdad

supuesto porque es verdad es un texto posibilista es un texto que lo que hace desarrollar posibilidades que ya están contenidas en la ley por eso por esas razones y porque siempre como digo hemos estado de acuerdo no con lo que pretendía la iniciativa
del que trae origen este texto sino con lo que de verdad son la introducción de cláusulas sociales en la contratación es por lo que hemos votado favorablemente eskerrik asko llanos andrea

en principio es el primer debate que tenemos acerca del desarrollo de la ley de vivienda que como he sabido se aprobó en esta cámara el año pasado a impulso de los socialistas y con el concurso como de unión progreso y democracia y de euskal herria bildu

necesidad de desarrollos reglamentarios y una de las primeras cuestiones con las que ha encontrado también una cuestión a resolver es precisamente la creación de diferentes registro que según la ley de tasas de euskadi grabaría efectivamente todas aquellas actuaciones que tenga

en estos registros registro de protección pública de solicitantes de vivienda registro de inspecciones técnicas hay varios registros por lo tanto de lo que se trata es de no grabar todos estos actos registrales que son obligatorios y por lo tanto pues en fin estamos a favor naturalmente de la eliminación de dichas tasas
y nos congratulamos de que haya un acuerdo suficiente como para que esto vaya a prosperar nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

de la iniciativa propuesta que tienen ustedes en sus manos en segundo lugar

como es el relativo al cobro de tasas por las inscripciones en los numerosos registros

y en tercer lugar porque no se ha producido ninguna dificultad entre los grupos políticos

aunque formalmente este procedimiento de lectura única supone la imposibilidad de presentación y debate de enmiendas y por tanto una restricción en el ejercicio del derecho de participación de todos los grupos en este caso la citada restricción entendemos que no se ha producido

hemos negociado un texto entre todos los grupos políticos y se ha alcanzado un consenso total por todo

por prestar su apoyo en la tramitación en la presentación y aprobación de esta iniciativa por la cámara eskerrik asko eskerrik asko aldaiturriaga jauna

señora presidenta desde el escaño simplemente para decir que efectivamente nosotros conocíamos el texto incluso antes de que se presentase dimos nuestra conformidad con el mismo por lo tanto estamos

del mismo porque es verdad que nuestro grupo no estaba a favor de la ley de vivienda teníamos muchas dudas sobre su seguridad jurídica como después se han visto esas dudas corroboradas pero es verdad que con alguno de los puntos como la creación de los registros sí estábamos de acuerdo que de acuerdo con el decreto

lo que venimos es a eliminar esas tasas porque no las consideramos de recibo por lo tanto vamos a votar favorablemente